y presencia en los mercados globales bi mila hemeretziko urrian jaurlaritzak

es un referente a nivel internacional las empresas no suizas participantes del grupo elaboran sus productos normalmente con alto valor añadido en sus propios países

en euskadi nos garantizamos y apostamos por los productos lácteos de calidad y km cero el sector lácteo con una alta contribución económica

y con un alto nivel de estructuración es un sector estratégico que contribuye de forma fundamental al mantenimiento de las zonas rurales de euskadi pero sabemos que es un sector

operazio honek duen eraginagatik se ha decidido por tanto tomar la participación del siete coma treinta y uno por ciento de kaiku corporación alimentaria

kaiku corporación alimentaria es la matriz del grupo kaiku donde uno de los participantes más relevantes es la cooperativa

un setenta y tres coma cuarenta y siete por ciento de la participación por tanto entendimos oportuna la compra de ese siete coma tres por ciento sabiendo que

y que es un sector además el de la alimentación donde estamos teniendo unos resultados realmente interesantes y que puede ser un nicho importante de oportunidad

además de por eso porque es un nicho relevante de actuación pues porque

de primerísimo nivel que permite que kaiku esté entre las mejores empresas del sector alimentario y que tenga un futuro realmente relevante eta gainera

orduan eurekin en la manifestación faltaban dos partidos los que niegan los derechos civiles y políticos tanto de cataluña como de euskal herria uno de ellos es

hemen no creo que haya alternativa mejor a lo que pueda ser un esfuerzo por ensanchar la vía vasca acordar aquí y ensanchar ese acuerdo

errezezio aurreikuspenak konfirmatu egiten dira cuáles creen que pueden ser los impactos de esta incertidumbre en euskadi

eskerrik asko legebiltzar buru andrea señor martínez yo no he ocultado los impactos que ya

ni tampoco he ocultado mi preocupación en el debate de política general concretamente presenté el escenario

en incidencia o con incidencia en temas básicos dificultades en las empresas precariedad en el empleo y brecha salarial niveles de pobreza y desigualdad social

por lo tanto señor martínez creo que he venido planteando también estas sombras que pudieran cernirse sobre euskadi por incidencia de lo que ocurre también a nivel global

nos corresponde ofrecer soluciones y creo que aquí el gobierno vasco también está ofreciendo soluciones eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna

lehendakari la mejor manera de hacer que euskadi no se vea afectado o lo sea

se está viendo envuelto es aplicar políticas que por un lado nos permitan avanzar hacia un modelo económico robusto y en consonancia con las exigencias

pero también que este nuevo modelo ofrezca oportunidades y bienestar a la ciudadanía galdera da

principalmente la automoción y el petróleo quienes han ralentizado las exportaciones es evidente que urge la transición en estos dos sectores para la economía vasca

parece no urgir en sus presupuestos porque en las partidas avanzadas el martes bajo el nombre de euskadi sostenible no hay ninguna sola partida específica o empleo que respondan a los criterios de emergencia climática que su gobierno

proteger a nuestras empresas de la crisis no es solo rescatarlas es prepararlas para los retos de futuro eta zuk esan duzu askotan krisi bati

ehuneko hamararen gainetik las tendencias no son buenas

tenemos un mayor número de personas desempleadas que en dos mil ocho y sobre todo en una situación de precariedad

la realidad es tozuda estos son los números con los que jugamos para dos mil veinte y a los que los presupuestos tienen que dar respuesta desempleo y precariedad se traducen

y permítame que también traiga aquí los datos publicados ayer por el eustat que ilustra perfectamente la euskadi de dos velocidades que va a tener que afrontar una posible crisis económica

bikoitza berrogei mila euro baino gehiago señor lehendakari permítame que insista en este punto

de las consecuencias de la crisis económica que se avecina el próximo año

debería pensar qué utilidad están teniendo esas inversiones para no dejar a nadie atrás

ponga usted en marcha políticas valientes innovadoras que conformen un escudo ante la crisis pero también que no demore más las transformaciones de calado

hacer frente a los retos del siglo veintiuno no hablamos solo de grandes titulares
hablamos de acabar con la euskadi de dos velocidades eskerrik asko eskerrik asko denbora amaitu zaizu

eskerrik asko legebiltzar buru andrea señor martínez yo no sé cómo lee usted los titulares o determinadas referencias si
haciendo también la comparativa en relación a los datos trimestrales los interanuales no sé cómo hace usted la interpretación de los titulares pero en todo caso

o que en todo caso hiciera también referencia a los indicadores que los estudios europeos dicen que euskadi es la sociedad más cohesionada o la región más cohesionada por ejemplo no yo no he ocultado el impacto en euskadi tampoco quiero ser alarmista y he dicho antes que nos corresponde ofrecer soluciones por ejemplo

a un contexto global nosotros hemos ofrecido la visión sobre el futuro de europa que aportamos el pasado año y realiza propuestas en los ámbitos de la europa social competitiva

estamos en un tiempo en el que podemos hacer efectivas estas propuestas en los presupuestos que hoy hemos registrado también aquí en el parlamento y se orientan en esa dirección precisamente

los riesgos de la incertidumbre son ciertos como también son las oportunidades de respuesta constructiva que ofrecen por ejemplo el proyecto de ley de presupuestos generales para el año que viene nuestra voluntad es aprovechar esta oportunidad sería bueno también que hiciera referencia a los datos que

en la comunidad autónoma del país vasco pero en todo caso nosotros hemos planteado un presupuesto social que prioriza

una propuesta que apoya de forma transversal la igualdad de mujeres y hombre con actuaciones valoradas

con un enfoque medioambiental y económico con quinientos diez millónes

y la innovación con cuatrocientos ochenta y seis millónes nuestro objetivo es crear más y mejor empleo quince mil trescientos empleos este año y once mil quinientos el que viene vamos a cumplir el compromiso de incentivar

yo creo que tenemos bases suficientes como para lo que pueda ser un trabajo compartido también en base a los presupuestos eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna gai zerrendako laugarren puntua

enborra euskadiren berezitasunaren bermea hoy veinticinco de octubre

cuarenta años un estatuto que ha hecho posible que euskadi sea hoy la expresión política de la unión voluntaria de vascos y vascas que piensan y sienten diferente porque en el fondo

un pacto entre diferentes que respetan mutuamente esas diferencias y resuelven nuestros problemas con las herramientas que les brinda ese estatuto que es la máxima expresión de nuestro autogobierno euskadi nunca fue tanto como con el estatuto de gernika un estatuto que significa a nuestra singularidad como debe simbolizar también el respeto y la convivencia entre diferentes es la puerta que nos abre a la posibilidad de conquistar nuevos derechos propios en base a nuestra capacidad competencial reconocida por el estado y recogida por el propio estatuto

es la ley de vivienda que no deja de ser un pacto también entre diferentes

pionera en el estado una ley que nació con vocación de dar un salto cualitativo como garantía de dotación de una calidad de vida

la ciudadanía vasca una ley de vivienda que al igual que otros derechos

entre iguales una sociedad de futuro de oportunidades una sociedad que protege al más débil solidaria que trabaja para que nadie se quede atrás durante todos estos años hemos sido capaces de construir un sistema de protección un sistema al servicio

que ha encontrado también en esos servicios la base de un estado de bienestar del que sentirse orgullosos por eso queremos seguir avanzando en nuestro autogobierno

del estatuto de todos y todas como hemos hecho por ejemplo a través de la ley de vivienda un estatuto que permita seguir con la modernización de euskadi que permita mejorar nuestro servicios como decía ampliar nuestro sistema de protección

hacia una sociedad más igualitaria que nos permita incorporar los derechos conquistados como esta ley de vivienda y sentar la base para incorporar los derechos que están

entre diferentes que se unen por encima de su manera de sentirse vasco de concebir nuestra identidad política un estatuto que una y que no divida por eso es importante que sigamos desarrollando nuestras leyes como base en la que se sustenta esa euskadi del futuro mientras algunos han querido durante años dar muerto el estatuto y a su negativa de celebrarlo ese día así lo evidencia

demuestran que la verdadera clave del bienestar de los vascos la mejora de nuestra calidad de vida el avance de nuestros derechos reside no en tratar de superar la legalidad sino precisamente en sacarle el máximo partido en exprimir ese autogobierno al máximo en sacar todas sus potencialidades

de la ciudadanía hoy tenemos la ley de vivienda más avanzada de españa porque los socialistas nos empeñamos en dotar al gobierno vasco de una herramienta útil

un hogar digno y los datos demuestran que fue un acierto esto es hacer país esto es patriotismo de verdad por eso yo le pregunto cuál es el balance que hace
del desarrollo de la ley de vivienda a los cuatro años eskerrik asko eskerrik asko andueza jauna erantzuteko arriola jauna zurea da hitza

gracias señora presidenta señor andueza efectivamente

en que el estatuto de autonomía es bastante más que un listado de competencias es un proyecto de convivencia

para la ciudadanía vasca y supone un orgullo para mí como lo supuso hace diez años

de un gobierno que existe gracias precisamente a ese estatuto y como socialista

que han permitido construir la euskadi social y plural que hoy disfrutamos hace cuarenta años

de la euskadi que queríamos con ese marco estatutario se podía haber diseñado un modelo u otro pero optamos

que prevé la constitución cuando se habla de la agenda vasca suele en muchas ocasiones a asociarse a contenidos más políticos

la agenda social vasca que es la que nos ha permitido crear una red de bienestar por la que todas las personas sean quienes sean y piensen como piensen son aprendidas por igual en los centros de salud en las escuelas en los servicios sociales

como el concierto económico que nos permite gestionar noventa y cuatro de cada cien euros

que ha avanzado en progresividad y equidad así que lo importante como le decía al principio no era solo el listado de competencias

y además hemos querido hacerlo huyendo del conflicto y de la confrontación que haya diferencias distintas visiones de afrontar el problema

a la democracia lo obligado en un sistema democrático es encauzar esas diferencias mediante el diálogo

a las normas y la ley de vivienda a la que usted se ha referido se ofrece como un buen ejemplo de esa agencia social vasca y de esas pautas de actuación es una ley

pero se hizo pisando terreno firme y sólido y buscando también

ni en políticas de suelo ni en políticas de vivienda pública gracias a ellas se han construido

un tercio de ellas promovidas por el gobierno vasco aunque queda mucho camino por hacer es verdad que en estos cuatro años transcurridos

para empezar en que nadie cuestione esta ley ni ningún partido

hoy día cuando tenemos reconocido el acceso a la vivienda como derecho

familias reciben en euskadi cobertura de sus distintas administraciones públicas ya sea mediante una vivienda pública o mediante una prestación económica para pagar una parte del precio del alquiler en lo que va de legislatura

el parque de alquiler protegido tras el parón que supuso la crisis ronda ya los veintitrés mil pisos si se suman los de los ayuntamientos

desde el gobierno creo en conclusión que la ley de vivienda es un buen ejemplo

y del camino que debemos de seguir en el futuro eskerrik asko eskerrik asko

señor lehendakari y señoras y señores consejeros señorías muy buenos días

el sistema nacional de becas y yo entiendo que usted tiene derecho aunque sea el lehendakari

y esto es lo que le pregunto y no sé qué le parece a usted de hacer pedagogía de cómo funciona un estado de derecho que hay unas leyes que se tienen que cumplir en los tribunales que las tienen que aplicar los epítetos fueron muy duros dijo usted que la sentencia era nefasta y que el proceso

en su persona que suele usar un tono moderado yo sinceramente creo que eso le aleja del papel institucional que tiene que representar y de la necesaria pedagogía

eskerrik asko legebiltzar buru andrea señor alonso he estado muy atento a su intervención no he notado ninguna pregunta

en todo caso señor alonso sin lugar a dudas creo que su pregunta es retorica porque conoce usted bien la respuesta sin lugar a dudas

la política la democracia y las instituciones también merecen respeto eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna alonso jauna zurea da hitza

yo le pregunto el nacionalismo que usted defiende es el mismo nacionalismo que el de los independentistas de cataluña

asume los conceptos las ideas que acaba de asumir en la pregunta de la señora agirre está usted tomando partido por qué toma partido usted señor lehendakari

estamos asumiendo el campo mental que nos están planteando aquí al imperio de la ley

aquí a impongo yo mi voluntad por encima de las leyes se le llama democracia aquí se afirma que hay unos enemigos que son los que por lo visto

y al partido socialista usted comparte esa afirmación a tiros

y usted sigue sin condenarlo eso es lo que había hay que tener cuidado no podemos seguir esa vía de cataluña

que hay ahora en cataluña y me preocupa profundamente que usted quiera tomar partido

punto por punto el manifiesto que planteó la plataforma gure esku dago que nos quiere llevar a ese camino de cataluña

de moderación que iba a mantener una posición de ecuanimidad y me preocupa que esté tomando partido por un determinado

que quiebra la convivencia de esa comunidad y la divide hoy efectivamente se cumplen cuarenta años del estatuto

estamos valorando lo que ha supuesto para la sociedad vasca pero el estatuto que es nuestro punto de encuentro porque nosotros somos diferentes pero tenemos un punto de encuentro algo que nos une es también nuestra garantía el estatuto nos protege el soberanismo es el caos señor lehendakari y lo estamos viendo en cataluña el estatuto es la seguridad la garantía de que convivimos debemos protegerlo no movernos de ahí el estatuto

o de la constitución y por eso me preocupa mucho la actitud que usted está manteniendo en relación con cataluña me parece escasa le pido más implicación en hacer pedagogía

que se ha levantado contra el derecho contra el estado y que han puesto la convivencia ahí hay unas algaradas que todos los días están causando

a los ciudadanos de cataluña ahí se está rompiendo algo y el camino nuestro no es el camino de la ruptura es el camino de la unión que nos garantiza estos cuarenta años de estatuto señor lehendakari

mire señor alonso creo que tenemos una responsabilidad pública de nuestras actuaciones y declaraciones

que no están en duda y le aseguro yo que yo no lo voy hacer ni siquiera en relación a lo que pueda ser la opción ideológica del partido popular por responsabilidad y por respeto mire yo no termino de entender

el firme rechazo condena de la violencia porque es radicalmente incompatible con una solución dialogada la convivencia y con el respeto que merecen los derechos humanos toda mi trayectoria política institucional y personal he condenado la violencia es una convicción íntima en relación a cataluña

hemos realizado aportaciones y propuesto salidas sin traspasar el respeto a personas partidos

hemos manifestado que el proceso político y judicial el proceso político y judicial ha constituido un despropósito y que su desenlace ha sido nefasto no la sentencia no he dicho en relación a la sentencia

que ha sido nefasto he dicho que la judicialización de la política solo conduce como en este caso a resultados negativos

es imprescindible una estrategia trasversal que apueste por el diálogo y el acuerdo

y no se trata de un problema solo catalán es un problema de la estructura territorial del estado

se ha demostrado que no funciona señor alonso es necesaria una mesa de negociación política que asuma las pluralidades internas en el estado

con tiempo con altura de miras es necesario señor alonso canalizar la solución hacia el diálogo transaccional diálogo transaccional el pacto

y la cuestión territorial en el estado no se resuelven con estridencias autoritarias ni con firmezas sobreactuadas de intención electoralista

responsabilidad de respeto a las opciones ideológicas también la que yo pueda defender como yo lo hago con la suya

de diálogo y de voluntad y le invito por lo tanto señor alonso a usted y a su partido a que sumen en esta dirección que contribuyan a encauzar una solución dialogada la única que puede dibujar

y no con recursos a lo que pueda decidir una mayoría en el parlamento como es el caso del parlamento catalán eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna

los territorios ocupados por parte de israel en territorio palestino eskerrik asko

ha realizado un análisis previo de legalidad y de ética es una práctica habitual en todos y cada uno de los proyectos internacionales en los que participa

nos estamos refiriendo a una empresa multilocalizada con más de cien años de trayectoria
desde luego uno de los aspectos clave ahora y antes también pero ahora más que nunca son los derechos humanos y la ética profesional eskerrik asko eskerrik asko

señora tapia claro que caf es una de las principales empresas de nuestro país

tanto para la economía como para el empleo y todo el mundo seguramente hemos sentido orgullo cuando estando en otra ciudad del mundo vemos y nos montamos en un tren de caf

palestinos ocupados ilegalmente por israel qué vamos a sentir qué va a sentir usted después de decir estas palabras

pero le vuelvo a preguntar por su opinión no por la competencia del gobierno ni nada parecido por su opinión y si va a trabajar con la empresa para que se retire de ese proyecto porque por si fuera poco tenemos cerca del uno por ciento o más del uno por ciento de las acciones

ni siquiera con ese porcentaje quiero ser yo ni mi grupo quiere ser cómplice ni creo que la mayoría de los vascos de esta ilegal obra la directora de la unrwa afirmaba que había confiscaciones de tierra

desde hace décadas allí para construir estos asentamientos que ahora

tienen que soportar controles arbitrarios de horas y humillaciones continuas para moverse en el día a día de qué sirve señor lehendakari

con los problemas que luego esta intenta paliar nos hemos pronunciado por unanimidad en este parlamento contra los abusos de israel seamos coherentes sean coherentes y no nos hagan cómplices de estas violaciones de los derechos humanos y sí son violaciones del derecho internacional

el poder ocupante no puede deportar o transferir población hacia el territorio ocupado prohíbe la destrucción de propiedad privada y de propiedad pública en territorios bajo ocupación viola la resolución dos mil trescientos treinta y cuatro nada más y nada menos que del subconsejo de seguridad de naciones unidas

internacional y violan también la opinión de la corte internacional de justicia donde dice que los estados tienen la obligación

de estos asentamientos y que tiene la obligación de no prestar ayuda ni asistencia para el mantenimiento de los mismos también los principios rectores de naciones unidas que tanto

en estos tipos de asentamientos que violan palabras de la unión europea

por desgracia persiste en continuar con su participación no va a ser elkarrekin podemos quien lo haga va a ser la propia naciones unidas

la que la incorporará a una lista negra de empresas multinacionales que violan el derecho internacional

va a trabajar con caf para que se retire de ese proyecto porque hay empresas

internacional creo que si no va cambiando la opinión de este gobierno vasco de lo que a primera

de ética y de coherencia de políticas porque por compromiso con los derechos humanos por coherencia con el desarrollo humano sostenible en defensa del empleo en defensa de caf y de los trabajadores y las trabajadoras de caf tenemos que parar

esta ilegalidad y tienen que hacer su parte y le pregunto lo van a hacer

solidarizado infinidad de veces con el pueblo palestino de nada sirven todas esas declaraciones si luego colaboramos por acción o por omisión
con la ocupación de israel eskerrik asko martínez zatón jauna

se lo he dicho en mi primera intervención señor martínez nos encontramos ante una empresa que apuesta de manera clara e inequívoca por el desarrollo sostenible

sostenible y usted bien sabe que dentro de esos objetivos del desarrollo sostenible están desde luego responder a los retos del cambio climático

una empresa precisamente de fabricación de material de transporte eléctrico claramente los cumple con el cuidado del medio ambiente y de los recursos naturales por ende la ética y la transparencia los derechos humanos o la igualdad por tanto estamos trabajando con muchas empresas con las asociaciones empresariales en el cumplimiento y en la incorporación de los objetivos de desarrollo sostenible en todas las actuaciones tanto del estado como actuaciones internacionales

pero desde luego ante los marcados escenarios con realidades geopolíticas muy diferentes muy complejas incluso claramente

no es de recibo a nuestro juicio exigir únicamente a un agente empresarial o a varios lo que mandatarios

diplomacia política no es capaz de resolver por tanto nuestro trabajo como gobierno vasco es cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible y hacérselos cumplir

lo haga y lo están haciendo por tanto en ese mismo sentido vamos a continuar trabajando eskerrik asko

hoy euskal herria bildu trae a esta cámara un tema tabú y digo un tema tabú porque vamos a hablar hoy de la marca rioja alavesa y

pero eso no garantiza que se esté hablando y que estemos sufriendo un ataque en toda regla

por parte del consejo regulador como es querer quedarse con la marca rioja alavesa como es apropiarse usurpar y robar en definitiva la marca rioja alavesa una marca

yo diría que es una noticia más que importante sobre todo porque marca porque condiciona la estrategia a futuro que tenemos pensado o que entiendo que el gobierno tiene que tener pensado a futuro para la comarca riojano alavesa y voy a hacer un poco de historia digo que han pasado veinte años

en el registro de marcas y patentes en españa han pasado veinte años durante veinte años el gobierno ha estado mirando a otro lado parece que a nadie le importaba que el consejo regulador fuese el dueño de la marca y han pasado los veinte años

se ha atentado contra una historia contra una comarca históricamente con yo diría que con necesidad con urgencia de reclamar

es quien es dueño hoy en día y quien puede decidir qué hacemos o qué no hacemos con la marca rioja alavesa durante estos veinte años

que ya está bien que el consejo regulador la denominación rioja pues no les sirve no les funciona y que tienen que empezar a pensar en diferenciarse en ser autónomos porque la calidad de álava

supera la anterior y que ellos están por la labor de salirse del consejo regulador rioja en este momento en el dos mil diecisiete este movimiento

una nueva denominación de origen efectivamente no se consigue pero el consejo regulador en pos de un buen acuerdo en pos de hacer las cosas bien les dice bueno venga vamos a llegar a un acuerdo porque

y en este año dos mil diecisiete en agosto

se llega a un acuerdo un acuerdo en el que efectivamente se plantea aumentar la diferenciación se les da un poco de lo que estaban pidiendo gracias a ese todo movimiento a esa pelea que han pasado durante años

se marcha a europa y nada más no solamente no miraba a españa sino que decide que va a registrar la marca rioja alavesa ya en europa o sea nos estaba dando por un lado palmaditas

a europa y registro la marca y digo que rioja alavesa sigue siendo mía para que nadie se mueva para que nadie se salga del tiesto

yo entiendo que es mala fe yo entiendo que es un despropósito y yo entiendo que el gobierno vasco en ese momento tenía que haber dicho hasta aquí hemos llegado

nadie ha llegado hasta aquí esto es un problema político que no se ha tenido en cuenta y que convierte en papel mojado cualquier hoy además

estatuto hemos hablado de cosas que somos competentes para hacer pero en este tema no se hace nada se deja que el consejo regulador sea dueño y señor de la marca rioja alavesa

gobierno vasco y diputación foral de álava no se mueven están callados y quién pone un recurso pues en principio a quien le correspondería la cuadrilla rioja alavesa efectivamente pone un recurso contrata un bufet privado de abogados

por un defecto de formas no se acepta estamos ya en el año dos mil diecinueve cuando

ya es propiedad del consejo regulador de rioja dueño y señor de todo esto

para diferentes tipos de categorías pues podemos decir que la registra para vinos bebidas bolsas etiquetas paquetes así dicho parece que no es nada pero es tan sencillo como decirme que cuando el baskonia o el alavés juegan y ponen un gran cartel que pone rioja alavesa

porque si no no lo pone yo a eso le veo un pelín de riesgo simplemente porque el consejo regulador nos va a decir cuándo sí

hacer camisetas o poner un cartel grande en el baskonia no solamente es un poquito de riesgo sino que encima he intentado hacer una comparación y he pensado bueno y qué pasaría si el corte inglés decide que la marca euskadi basque country es de ellos yo creo que el gobierno diría no no no no que la marca euskadi basque country es nuestra

rioja alavesa está ahí abajo es verdad que está un poco al sur es verdad que está lindando con españa pero es verdad también que es una comarca a la que tenemos que defender como gobierno vasco que somos porque se lo merecen y porque están peleando más que nadie solamente para buscar esa diferenciación que de momento no la están consiguiendo

un montón de artículos pero me voy a quedar con uno me voy a quedar con uno y

necesitamos una marca fuerte para rioja alavesa joe no puedo estar más de acuerdo tiene razón

o es que no estamos defendiendo lo mismo de quién es deber

de vigilar los intereses de la comarca rioja alavesa del consejo regulador del gobierno de la diputación de la propia cuadrilla

efectivamente de feria en feria allá nos presentamos hablamos de excelencia hablamos de que somos los mejores produciendo vino alavés

mientras hemos visto como el consejo regulador jugaba sucio muy sucio de un día para otro intentando hacerse con algo que no le corresponde y mientras

la identidad incluso diría cuando juegan con ellas cuando una marca comercial

un nombre de una comarca histórica es un pelín grave

espero que me digan por fin hemos cogido el toro por los cuernos vamos a hacer vamos a trabajar vamos a recuperar esa marca y dese luego no vamos a dejar en manos de la cuadrilla

bastantes cosas tienen que hacer como para dedicarse a contratar abogados para poder defenderse de sí mismos y voy a decir otra la diputación foral de álava da creo que son cuarenta y cinco millónes cada diez años hablaríamos de cuatro millónes

para defenderme y para quedarme con vuestra marca la sensación que yo tengo así a primera vista es que se están riendo

desde luego es un atropello no es el único efectivamente no es el único de la denominación de origen rioja del consejo regulador no es el único pero es el más sangrante porque que no quiera que

qué nos va a decir tengo aquí una foto de estos días cuando daban premios a los grandes bodegueros de rioja

la tercera parte son alaveses y la parte de delante son el gobierno de rioja

pues que la denominación de origen rioja si no fuera por los vinos alaveses tendría un problema tendría un problema porque su apuesta sigue siendo dinero sigue siendo económica sigue siendo a cantidad

pero por todo lo que estamos viendo encima de la mesa yo diría que el consejo regulador

firmando diciendo que son suyos sin más la pregunta es clara qué va a hacer el gobierno para defender a rioja alavesa a todos los dinosaurios a todos los fantasmas a todos los ataques que tiene encima de la mesa eskerrik asko

eta zentzu horretan egin dugu egin duguna nos hemos opuesto con éxito las administraciones vascas en la pretensión de que el consejo regulador de la rioja registrara en el estado la marca rioja alavesa no solo para el caso del uso del vino

más allá de lo que es el producto del vino esta defensa se ha resuelto con éxito y no se consiguió que en el estado fuera así utilizada y solamente permanece la de hace veinte años la de la categoría denominada treinta y tres que es la del vino sin embargo

regulador intenta el registro de la marca en europa y ante esa situación volvemos a trabajar de forma conjunta a través de la contratación sí es cierto de la cuadrilla rioja alavesa

en ese ámbito en el ámbito europeo por qué porque corresponde competencialmente a realizar las oportunas gestiones a álava y en concreto a la propia cuadrilla que es la que debe realizar esa no obstante no lo ha realizado sola como usted pretende señalar en este caso sino que lo ha hecho trabajando de la mano de lo que es la diputación foral y también

de rioja alavesa no ha prosperado sí es cierto y el registro ha quedado en este momento dentro de la referido al vino y a otras actuaciones como usted bien ha referido todo ello apunta a que desde el año dos mil diecisiete y dos mil dieciocho

con el objetivo de defender no solo la marca que ya tenía sino ampliarla a otros productos

que se encuentran dentro de las categorías veinticinco y cuarenta y uno eso hace referencia además de todo lo que usted ha dicho incluso

y a otros ámbitos que desde luego resultan un tanto extraños cuando los consideramos así el gobierno vasco se ha mantenido crítico y lo hemos

conjunta ahora bien una vez que se ha recibido por parte de la unión europea la negativa al recurso presentado por

dentro de la denominación de origen rioja del consejo regulador esta propiedad nos corresponde utilizar otro tipo de herramientas se ha tratado de defender la posición de cuadrilla de rioja alavesa en base a diversos argumentos entre los cuales aparecía concretamente el que la marca rioja alavesa estaba asociada a la propia cuadrilla era el argumento más importante

de dominios web no ha sido posible llegar a esa situación en la que se

de la cuadrilla llegados a este escenario desde luego entendemos que la marca rioja alavesa tiene que estar a disposición

vascas del uso intensivo de esa marca depende las actuaciones que se vayan a llevar a cabo en diferentes categorías por supuesto y tiene que estar en manos de instituciones vascas

lo que nos corresponde es como mínimo es la primera de las actuaciones que vamos a llevar a cabo exigir oficialmente al consejo regulador que ceda

vamos a decir en buena fe la regulación y el uso de la marca rioja alavesa en todas las categorías administraciones y empresas vascas y en concreto la del vino que sea dentro de lo que hemos venido a estructurar

en la fundación hazi lo que denominamos la basque wine office y el resto de los ámbitos que queden

es la primera actuación que debemos emprender dentro de una negociación entendemos que de buena fe pero hay que iniciarla por ahí porque una vez que sí se ha ganado el recurso en el estado pero no en europa nos corresponde trabajar

consigamos ese uso y regulación de la marca dentro de la comunidad autónoma porque como usted bien decía es defender un hecho diferencial simplemente y que desde luego en el caso del vino está muy claro a partir de ahí una vez se haya emprendido esa actuación y de la respuesta del consejo regulador emprenderemos otras actuaciones sin ningún lugar a dudas para conseguir que el uso de la marca
y sea utilizado por empresas e instituciones vascas eskerrik asko eskerrik asko

le veo optimista señora tapia le veo optimista y además habla usted de buena fe en consejo regulador pues no será por lo que nos ha demostrado hasta ahora porque buena fe lo que es buena fe el consejo regulador

nunca diría una cosa más este gobierno tiene un representante en el consejo regulador con voz es que nadie les ha hecho caso es que nadie ha dicho nada en alto es que han ido ustedes a hablar allí algo no lo han hablado o

o al consejo regulador le da igual lo que el gobierno vasco diga también puede ser otra opción buena fe del consejo regulador

la marca no es nuestra si está claro que no es nuestra tenemos el nombre que efectivamente es histórico además es el nombre histórico de una comarca alavesa efectivamente

eso es así además es que no solamente estamos hablando de una marca de vino estamos hablando de un nombre histórico desde hace tres siglos o sea félix maría sáenz de samaniego ya lo usaba en sus escritos por ejemplo

quiero decir es que viene el consejo regulador se viene arriba y se la hace propia y veinte años el gobierno mirando hacia otro lado

hoy al parlamento pero hace pocos días a las juntas generales de araba también he de decir oye perdonarme alguien sabe algo de la marca rioja alavesa

la sensación que tengo me va a disculpar señora tapia es que los avestruces meten la cabeza de la tierra y eso es una estrategia arriesgadísima y más ahora cuando hace pocos años había quinientos bodegas familiares y hoy tenemos doscientos o sea estamos cayéndonos

estamos yendo hacia abajo mientras este gobierno no se ponga las pilas no plantee una estrategia de verdad de cara a futuro y piense que esto no es solamente en la recuperación de una marca no no no estamos hablando de cohesión social

primario en este caso si quiere de un mantenimiento que es necesario pero que necesita de una estrategia futuro la estrategia no puede funcionar según lo que el consejo regulador nos diga o no nos diga o funcione y vaya a hacer al día siguiente algo

tenemos que defender nuestros vinos tenemos que defender nuestras personas agricultoras que están ahí matándose y sobreviviendo malamente porque cuando hablamos todas las veces de excelencia

que no va bien que nos estamos quedando sin bodegas pequeñas y familiares

entonces un poco de por favor entonces de buena fe lo siento hoy buena fe ayer creo que lo dije también en estos mismos micrófonos

tenemos que ir de la mano pero desde luego cuando el gobierno vasco defienda de verdad no solamente confíe en la buena voluntad porque a mí eso me suena un poco místico la verdad no podemos confiar en la buena voluntad del consejo regulador tenemos que

no hombre no así que me alegro que usted me diga que va a hacer algo pero por favor no me diga que seguimos y seguiremos dígame que por fin

a asesorarles porque para eso este gobierno tiene las herramientas suficientes para hacerlo eskerrik asko eskerrik asko

eskerrik asko presidente anderea me sorprende señora lopez de arroyabe porque

el gobierno no ha hecho nada en veinte años y gracias a euskal herria bildu ahora se habla en las juntas generales y en el parlamento vasco es que ustedes han aparecido ayer es que ustedes no estaban en este parlamento y en juntas generales o se han enterado ayer que esto estaba ocurriendo y de verdad se han enterado ustedes ayer porque el gobierno ya

esta marca y la ampliación de la marca del vino por cierto que la propiedad es referida al vino

ya lo había defendido había ganado en el estado español lo ha defendido en europa lo ha perdido pero es que parece que son ustedes los que han nacido hoy

usted nos hecha algo pero de verdad hasta ahora no les he oído nunca hablar de este tema nunca ni en juntas generales ni en parlamento vasco luego son ustedes los que se han enterado ahora

vamos a aclarar cuando hablamos de buena fe cuando uno emprende una negociación con otro siempre hay que sentarse de buena fe y con voluntad de acuerdo y eso es lo que vamos a hacer exigir

de las empresas vascas y de las instituciones vascas aclarémoslo y lo vuelvo a aclarar en el tema del vino y en esos otros ámbitos que han pretendido ampliar pero desde luego en la denominación de la cuadrilla nos han metido y hay otros ámbitos en los que tenemos que utilizar la marca porque lo podemos hacer

se han extralimitado utilizando o pretendiendo utilizar la marca y la propiedad de esa marca en el ámbito del vino en el ámbito de los textiles de la papelería y demás como usted ha dicho

sí pero ahí no vamos a mezclar lo que está ocurriendo con las

con el campo con la forma de trabajar que tienen en rioja alavesa que por cierto se ha trabajado con la inexistencia a su juicio de una estrategia de país

quien ha emprendido una estrategia y ha puesto en marcha desde luego una serie de actuaciones no hace mucho tiempo en rioja alavesa luego por favor no niegue la evidencia pero eso no significa que no vamos a actuar y lo vamos a hacer ahora siempre vamos a emprender esa negociación con voluntad de acuerdo y si esa negociación no da frutos
habrá otras medidas que pondremos en funcionamiento no tenga la menor duda eskerrik asko eskerrik asko tapia

la bbc cuando emitía para europa empezaba así sus emisiones london calling

algo así como al habla londres al habla londres a la escucha de euskaltel

porque tal y como dijimos hace unos meses el centro de decisión de euskaltel está y las decisiones relevantes sobre el futuro de euskaltel se toman en londres y se comunican

no en el consejo de administración no en la junta de accionistas de euskaltel

cebarlo para venderlo cebar la empresa hacerla más gorda y más apetecible ponerla en el mercado estatal ponerla en el escaparate y hacer lo mismo que el que han llamado para presidir euskaltel

pelotazo y todos los accionistas lógicamente están contentos porque van a ganar dinero y esa es su función a ellos no se les puede pedir otra cosa no se les puede pedir que tengan visión de país ya dijimos en su momento que el señor ohare por ejemplo no puede plantearle

que va a tener cualquier mínimo compromiso con euskal herria o con la cultura vasca es que le corren a gorrazos o a bombinazos ya que estamos hablando

pero es que no pueden hacerlo el problema es por qué está en manos de esta gente

la red de fibra óptica que construimos y pagamos con dinero público por sesenta y ocho millónes se malvendió en agosto de dos mil doce por decisión del partido socialista y del partido nacionalista vasco con apoyo del partido popular

en el precio que puede tener esta red en el mercado y en la comparación que se puede hacer entre el precio por el que se malvendió

vender ahora en el mercado eta guk ere galdetzen dugu

el otro día recordaba en la radio un profesor de la upv que cuando ponemos con el decodificador de euskaltel

nos habéis venido hoy a hablar hoy aquí de la inversión en kaiku y la ponéis además como ejemplo y ahora que hemos estado hablando antes mi compañera eva que ella tiene vacas es como si vas a comprar una vaca o unas cuantas vacas y

pues si la operación de kaiku es lo que ustedes tienen para enseñar cómo trabajar el arraigo y asentar el arraigo pues

y se lo han cambiado a esta mano eso son juegos de manos y luego el consejero dice

ha vendido ustedes han cambiado de manos una propiedad que ya era vasca el siete por ciento vasco

el arraigo y no era una empresa cuyo arraigo estuviera en especial riesgo ustedes y van dos de dos porque en caf hicieron lo mismo lo que están haciendo es dar cobertura

porque han hecho dos inversiones y ya que estamos hablando de kaiku me permito el chiste fácil blanco y en botella leche

de desarraigo específico y en cambio en empresas como euskaltel donde no es que haya peligro sino que todas las alarmas y todas las luces rojas están encendidas desde hace mucho tiempo dicen que no pueden hacer nada que el señor erkoreka que está a su lado dice no no es que no puedo hacer nada que es una empresa privada ya ya sé que es una privada es privada al cien por ciento porque ustedes vendieron

que fuera así y ahora lo que les venimos a pedir es que decidan precisamente revertir ese camino

el futuro de una empresa tecnológica fundamental para este país el perder una empresa que puede ser tractora en esa transición hacia una

de la sociedad y del tejido productivo y yo lo que les pido es que ya que van a poner en marcha un fondo de inversión si es que lo ponen porque ahora están diciendo que en el primer semestre de dos mil veinte

pero a nada que las adelante se nos acaba la legislatura y el fondo todavía no ha empezado a funcionar y las únicas dos operaciones han sido dos operaciones

a ningún objetivo estratégico y que no cumplen esa funcionalidad de fomentar el arraigo

horiei por tanto lo que dice públicamente de la empresa es que euskaltel y usted lo dice también no se plantea hoy la venta de la red quien ha planteado la venta de la red es un socio sí es verdad

que mayor porcentaje tiene pero no es mayoritario tiene un veintiuno por ciento

son en el consejo de administración y con un veintiuno por ciento no se tiene la mayoría como usted bien sabe me ponía en duda que alguien que tiene un setenta y tres por ciento en una empresa no pone en riesgo el arraigo y no lo pone porque es una empresa seria pero en cualquier caso el veinticinco por ciento en euskaltel lo hemos dicho en más de una ocasión

ese veinticinco por ciento garantiza una serie de aspectos de los cuales hemos hablado en muchísimas ocasiones

como estamos preocupados tanto usted como yo en este caso porque vamos a hablar de lo mismo por cuál es la participación de euskaltel en el tejido productivo vasco y sus actuaciones

óptica y creo que las administraciones vascas han vuelto a acertar cuando siendo pioneras en la ampliación de esa red de fibra óptica ha decidido llevarlas

de la comunidad autónoma trabajando desde dos puntos de vista por una parte llegando a todos los polígonos industriales y ámbitos de desarrollo productivo y llegando hasta

pueda tener acceso a todas esas herramientas donde trabajando

unas actuaciones muy relevantes en lo que me corresponde como departamento desde luego toda la ampliación a polígonos industriales se ha trabajado se trabaja y se ha planteado diferentes tipos de soluciones precisamente de la mano de euskaltel ha sido un agente imprescindible para que eso hoy sea una realidad

la digitalización en general sino con llegar a esos núcleos donde no tiene precisamente muchos clientes pero entiende que son muy relevantes para garantizar el equilibrio territorial

proponiendo diferentes tipos de soluciones que no pasan todas por

es una de las quince empresas iniciales con la que se comenzó el trabajo con diferentes empresas

ha participado y participa en las tres ediciones anteriores y participa

en cada una de las convocatorias y no todas las empresas lo hacen ha formado parte tanto del comité de evaluación y selección como en contratar

su parte productiva evidentemente pero para colaborar con esas startup haciéndolas crecer y haciéndolas

siendo la referencia necesaria para esas startup para continuar

ha colaborado con cinco de ellas desarrollando cinco proyectos innovadores y precisamente dándoles esa referencia concreta qué más

quizá masivos y que no son estrictamente de desarrollo tecnológico pero que son relevantes para el país como son

también han demostrado que tienen un compromiso con este país en su desarrollo y en la masificación no vamos a decir universalización de esas tecnologías

al máximo número de personas y en estos momentos estamos trabajando otro tipo de iniciativas mucho más ligadas a esos ámbitos de digitalización empresarial

verán la luz en breve con una participación muy activa

por tanto su compromiso con el desarrollo tecnológico y con las empresas del país está siendo demostrado y se puede ver

y la garantía de permanencia de la sede en estos momentos está garantizada y que un accionista determinado por cierto irlandés ponga

con sus accionistas de ese fondo la posibilidad de venta de la red no significa que eso hoy sea una realidad eskerrik asko eskerrik asko tapia

arrisku bizian dagoela eta mundu guztiak hori badaki y usted no me tranquiliza señora tapia ni usted ni su gobierno me tranquiliza diciendo que

y sí está pasando y están pasando las cosas con una coherencia absoluta y en una dirección clarísima ustedes en el año dos mil doce dicen que vamos a vender la red de fibra óptica vamos a vender la red de fibra óptica pero tranquilos que no va a pasar nada porque en euskaltel es mayoritario en el accionariado con kutxabank todos tranquilos

bueno son un poco fondos buitres y tal pero sigue ahí estando kutxabank tranquis vienen los fondos buitres hacen el estropicio que hacen llega la salida a bolsa y dicen tranquilos necesita capitalización la empresa pero ya kutxabank no va a ser mayoritaria pero va a tener un treinta y pico por ciento

tranquis que sigue siendo el accionista mayoritario llega zegona por una operación de erauzkin un auténtico de aprendiz de brujo que ha desatado fuerzas que no ha sido capaz de controlar y la única pena que tenemos

con el riñón bien forrado con los muchos millónes que se ha sacado en euskaltel después del estropicio que ha liado e invoca al maligno y ya sabemos cómo acaban estas cosas porque ellos han metido a zegona

y lo último ya no sé he perdido un poco el hilo pero usted dice tranqui que no van a entrar a cuchillo

roja de juego de tronos y tranqui tranqui tranqui pero es que se ha ido cumpliendo

habrá cosas en los que nos equivoquemos como todo el mundo no quiero ser arrogante en esta cuestión pero es que repasamos

desde agosto del dos mil doce cuando se decide vender la red de fibra óptica en la que ya

no me tranquiliza para nada que usted me diga que no se va a vender la red de fibra óptica

ha pasado desgraciadamente lo que habíamos dicho que iba a pasar y no ha pasado lo que ustedes han dicho que iba a pasar tampoco me tranquiliza que hayan puesto al frente de euskaltel a una persona que se encargó de liderar con el mérito que se le quiera atribuir a una compañía de telecomunicaciones como jazztel y que luego la vendió

y esto lo hemos contrastado con fuentes conocedoras del sector que lo que se quiere hacer es precisamente lo mismo es decir poner a euskaltel en el escaparate del estado y luego venderlo

usted ha dicho que tiene el veintiuno por ciento y kutxabank el diecinueve y pico que les separa un uno por ciento

en acciones les separa un uno por ciento pero les separa algo mucho mayor y es que zegona tiene muy claro lo que quiere y tiene capacidad de hacerlo y kutxabank parece no tener muy claro o es lo mismo que quiere zegona lo que quiere kutxabank porque si kutxabank tuviera una estrategia clara esto no estaría pasando

otro día yo sigo sin distinguir que el fondo ekarpen o el fondo nuevo sean más o menos vascos uno que otro

que está haciendo absolutamente irresponsable de desinversión en este país no solo les separa uno por ciento les separa que zegona tiene una estrategia y además tiene aliados

y sorprendentemente en algunas de las decisiones kutxabank también se ha situado entre esos aliados yo le pido a usted hemos hablado de fondos de inversión y le digo que me ha presentado como ejemplo de esas inversiones una un poco chuchurría que yo no se la compro la de kaiku que no yo quiero que haga una inversión real

inversión que dé sentido a ese fondo de inversión de arraigo estructural con empresas estratégicas una inversión en euskaltel y que hable con kutxabank para que rectifique su actitud erigiendo una estrategia de país dentro del consejo de administración de kutxabank y que hable con las fundaciones bancarias

y que entre todos articulen una inversión significativa para entrar en euskaltel

empresa de telecomunicaciones al servicio no solo de los intereses económicos de sus dueños sino también del bienestar colectivo de este país eskerrik asko eskerrik asko casanova jauna

eskerrik asko en primer lugar yo no he dicho que no se va a vender la red

le digo como usted bien sabe que no se ha planteado siquiera en el consejo de administración que es quien tiene que tomar la decisión lo que va hacer zegona o lo que tiene en mente evidentemente ni usted ni yo lo conocemos

una cosa es lo que uno habla y otra cosa es lo que tiene en mente como usted bien sabe ahora bien

existen otros accionistas relevantes accionistas que desde luego es verdad que se han dado todos esos pasos que usted dice pero eso ha significado que euskaltel se ha marchado no

y además gracias a la colaboración del gobierno a otros muchos lugares donde es realmente importante acciones también está trabajando con el tejido productivo vasco sí está introduciendo nuevas tecnologías también

se las he planteado luego una cosa son los movimientos accionariales

las actuaciones a nivel de consejo de administración de movimiento de una entrada en fondos de la salida a bolsa son movimientos permítame la expresión financieros y otra cosa son los movimientos tecnológicos y creo que los tenemos que diferenciar porque

que pese a todos esos movimientos la empresa se encuentra y sigue comprometida con el país y trabajando nuevos proyectos

tiene un veintiuno por ciento y es el accionista más importante cierto ahora bien los compromisos adquiridos previamente los sigue manteniendo y va más allá

pero su compromiso sigue existiendo desde ese punto de vista pues un mínimo voto de confianza sí desde ese punto de vista desde el puramente tecnológico y de implicación con las empresas y vamos a ir viendo qué ocurre en el consejo de administración si esa operación se plantea o no y en qué condiciones sigo diciendo es cierto que tiene el veintiuno por ciento pero el veinticinco por ciento del arraigo y de una serie de aspectos tales como la sede social el mantenimiento del centro de empleo las actuaciones están

como que uno es de corto alcance de capital riesgo con una entrada y una salida entre cinco y siete años como máximo

creo que está claro cuál es la vocación de este gobierno y es entrar en la participación de muchas empresas las ponga usted en valor o no y creo que kaiku es una empresa que tiene mucho valor con vocación de permanencia esa es la diferencia si usted no lo quiere entender no lo quiera entender pero esa es la diferencia y creo que es muy sencilla o estamos cinco años y nos vamos

o nos quedamos con vocación de permanencia y creo que ese es el principal activo que tenemos que trabajar quedarnos con vocación de permanencia y también

en una empresa como kaiku que tiene un alto valor tecnológico y que un trabajo con su principal accionista nos puede llevar desde luego a lugares donde hoy no estamos pero tenemos posibilidades de estar y ahí también hay que hacer una apuesta hay que arriesgarse

hemeretzia eta gaude ehuneko zazpian por lo tanto pues estamos estancados en energías renovables esto no es una novedad y esto

y la cuestión es cómo podemos mejorar en el desarrollo de las energías renovables dentro de la estrategia energética de euskadi dos mil treinta

y según los últimos informes de seguimiento el último informe de dos mil dieciocho

regular regular tirando a mal se establecen en esa línea ele seis varias acciones varias iniciativas por un lado

de energías renovables no me voy a centrar en esa cuestión porque yo creo que usted ya ha salido en los medios diciendo que va a reactivarlo y bueno pues tendrá su recorrido hay una segunda iniciativa que es la promoción de los proyectos de energías renovables junto a las administraciones locales también es una cuestión que imagino que tendrán en marcha y el

potenciar la generación distribuida de baja potencia en esa cuestión ustedes hasta ahora han desarrollado una línea de ayudas

que viendo los resultados que han tenido también muestran un estancamiento

como en el número de proyectos que consiguen impulsar entonces

a mí me gustaría hoy hacerle llegar la importancia de la producción descentralizada de energía

por dos cuestiones hasta ahora el paradigma de la producción de energía por lo menos en los dos últimos siglos ha sido la de producirla de forma centralizada a través de unas empresas generadoras de energía pero ese paradigma está cambiando está cambiando por los nuevos tiempos está cambiando por las nuevas dinámicas sociales

los nuevos avances tecnológicos que existen ahora mismo la producción descentralizada es una alternativa sostenible y una alternativa justa

centralizada evidentemente al ser tamaños menores su impacto es menor usted ya sabe que aquí en euskadi tenemos una capacidad limitada de hacer producción centralizada y que además de tener ese potencial limitado

tengan una cierta oposición ciudadana esto es un tema que ha salido en este parlamento una y otra vez y que va a seguir ahí encima de la mesa entonces la producción descentralizada es más sostenible pero también es más justa porque lo que hace es que toda la ciudadanía tenga la capacidad toda la ciudadanía y todas las empresas tenga la capacidad de disfrutar

y que son inagotables y que son comunes como el viento y el sol y que puedan obtener un beneficio económico o un beneficio social

esa utilización de esos recursos inagotables entonces dentro de las alternativas

descentralizadas yo me voy a referir a tres cuestiones importantes por un lado el autoconsumo eléctrico por otro lado las instalaciones domésticas de energía solar térmica y por otro lado el nuevo concepto que nos viene de europa que son las comunidades ciudadanas de energía estas tres cuestiones me parecen claves en el desarrollo de la generación

y de ahí que le interpele acerca de ello sobre el autoconsumo eléctrico no le voy a decir nada que no se haya hablado ya en este parlamento también fue una alternativa proscrita

también hay que decirlo con un apoyo tácito del partido nacionalista vasco pero desde la primavera pasada hay un real decreto que permite el autoconsumo eléctrico

y a día de hoy ya vuelve a ser una realidad entonces me gustaría que usted nos dijera cuál es su postura sobre el autoconsumo eléctrico si van a hacer

sino un impulso decidido que es lo que nuestro grupo desea en esta cuestión que el autoconsumo eléctrico ya no sea una mera anécdota proscrita por las grandes compañías eléctricas sino que sea una realidad

desde hace un par de años viene preguntando sobre el funcionamiento de los paneles solares térmicos que tenemos en todas nuestras casas para calentar el agua caliente

no funcionaban el año pasado volvimos a pedir los datos y ha mejorado ahora mismo solamente tiene deficiencias graves el sesenta y tantos es decir dos de cada tres paneles entonces yo lo que le quería plantear es bueno viendo

los dos primeros lotes de instalaciones inspeccionados prácticamente no funcionan no voy a decir en su totalidad pero en su gran mayoría y que eso viene siendo denunciado por los propios instaladores y por las propias empresas

se va a plantear su departamento hacer algún tipo de campaña especial de inspección para comprobar que todas las instalaciones hayan llegado o no a su fecha de revisión

porque claro esto tiene una importancia enorme desde el punto de vista social por qué porque estas instalaciones están puestas en todos nuestros domicilios y también en las viviendas de protección oficial en viviendas sociales

que no funciones esas instalaciones implica que esa gente no se pueda estar ahorrando

de los costes de calefacción y eso tiene una incidencia enorme por un lado

de cientos y miles de familias tiene no solamente un componente ambiental sino que tiene un componente social

de que no nos limitemos a esperar a que a esas instalaciones les toque hacer las revisiones que legalmente les corresponden sino que tengamos una actitud

y por último tenemos las comunidades ciudadanas de energía que como he dicho es un concepto nuevo que nos viene de una directiva que ha entrado en vigor en junio de este año y

son asociaciones cooperativas u organizaciones sin ánimo de lucro que están controladas por

que se dedican a la generación distribuida de energía y que realizan actividades como gestor de red como suministrador de energía o como agregador a nivel local es decir que están orientadas al suministro energético de la ciudadanía a la ciudadanía

que a la rentabilidad económica entonces yo me gustaría saber si su departamento tiene una postura sobre estas comunidades ciudadanas de energía cuya transposición a la normativa estatal tendrá que venir en diciembre de dos mil veinte si las van a apoyar si las van a promover activamente si van a empezar a trabajar en este ámbito a nivel de las comunidades locales de nuestros municipios o ciudades o si de alguna manera

que no procede apoyar a estas comunidades nuestro grupo ya le adelanto sí considera que son una figura muy importante a la que tenemos que apoyar porque

añadidas a la producción descentralizada de energía y de alguna manera nos permiten ir hacia ese modelo que nuestro grupo siempre ha dicho más sostenible más solidario y más democrático de energía que el que tenemos en la actualidad en este país por lo tanto bueno pues estas cuestiones me gustaría que nos lanzara
su propuesta y nada más gracias eskerrik asko becerra jauna

martxan jarri dugu por tanto el compromiso del gobierno es actuar de forma directa

sus competencias y sus formas de actuar y nuestro compromiso se ha demostrado con en este momento la compra centralizada de electricidad con un cien por ciento de energía verde bueno en euskadi se están haciendo esfuerzos por tanto menores quizás de los que necesitáramos para llegar a esos objetivos planteados por europa pero se van dando los pasos y esperamos además que en los próximos años sean

es cierto que además y usted mismo lo decía tenemos capacidad limitada debido a nuestras características geográficas para generar

renovable no obstante se están emprendiendo también actuaciones como usted bien sabe

novecientos de ellas están aisladas en la red eléctrica es decir forman parte de ese autoconsumo del que estábamos

conectadas a la red eléctrica en conjunto son veintiséis megavatios

en este mismo momento además estamos trabajando con diputaciones

para que pongamos en funcionamiento más placas solares fotovoltaicas desde el eve se dispone de cerca

y vamos a intensificar la puesta en marcha eso supone que entre administraciones públicas tenemos el veinte por ciento de la energía solar fotovoltaica además como consecuencia de la puesta en marcha del real decreto

se regulan además las condiciones administrativas como usted bien ha comentado para el desarrollo

la actualidad hasta la puesta en marcha de ese decreto se encontraba un poco dificultada por tanto eso nos ha permitido o nos permite poder dar un impulso

al autoconsumo y la primera de las actuaciones que es muy sencilla pero que ya está en marcha desde abril a ahora es facilitar y comunicar el nuevo proceso

más sencillo una tramitación administrativa en plazo reducido para la puesta en marcha de nuevas instalaciones de autoconsumo esa es la primera de las actuaciones que digo es muy sencilla pero que nos permite también fomentar las nuevas posibilidades además

poner en marcha nuevas instalaciones renovables que no son muy importantes en cuanto a la energía que generan pero sí lo son a nivel de autoconsumo individual y a nivel de nuevo ejemplarizante por parte de todos y cada uno de los que vivimos en este país

impulsando nuevos proyectos y nuevas iniciativas en cuanto a comunidades energéticas es cierto en las que se pueda compartir energía como usted bien decía

y en la gestión y la creación de incluso redes eléctricas denominadas virtuales para la gestión de esa generación distribuida en función de la demanda para ello tenemos que poner en marcha la figura de un agregador de demanda que sea un agente activo en todas estas comunidades

tendrán oportunidad de verlo también en los presupuestos dentro del presupuesto del ente vasco de la energía existe un aumento importante de ese presupuesto con el objetivo de poner en marcha

más a nivel vamos a decir de una mayor generación como en las actuaciones de autoconsumo pero desde luego vamos a trabajar

energéticas está previsto además seguimos implantando el bidelek cuatro punto cero es decir

y mucho más inteligente que contribuya a la descarbonización de nuestro tejido económico

que pueda estar en la vanguardia de todo este tipo de tecnologías vamos a continuar con el aprovechamiento del

a través de un proyecto conjunto entre el eve y nortegas en el que el biometano va a jugar a futuro o entendemos que puede jugar al futuro y un elemento importante en ese mix

económico financiera y la viabilidad técnica para el aprovechamiento del biometano que se produce en los vertederos que ya existen en este momento en euskadi y

renovables pero también una sociedad participada por el ente vasco de la energía y eólicas de euskadi

energía eólica a un nivel un poco más importante y actualmente se está en fase de medición del recurso eólico existente para poder analizar cuál va a ser la mejor de las situaciones

iniciativa de un trabajo en común entre el eve y la sociedad y es un proyecto de energía solar que es el más grande de euskadi que duplica la capacidad de energía solar fotovoltaica que estará

megavatios en el que existen casi son veintidós empresas las que están implicadas en la compra de la energía producida por esa central por tanto también

una puesta en valor de ese consumo de energía renovable

y además en cuanto a producción térmica con energías renovables descentralizadas existen varias iniciativas que continuaremos impulsando pero que ya existen en este momento

y el eve para promover el aprovechamiento de toda la biomasa forestal tanto local como más a nivel global que nos permita el aprovechamiento muy cercano

gestionar nuestra masa forestal y de gestionarla de forma adecuada con una especial incidencia en rioja alavesa con la poda de las en hidrotermia también desarrollamos una red de calor

y ya estamos además realizando estudios con el cluster de alimentación de euskadi para que la tecnología pueda ser desde luego aprovechada de la mejor manera posible y existen tres proyectos de hidrotermia también en los puertos de

desde el punto de vista de generación más masiva vamos a decir

más descentralizada más distribuida que nos permita ir aumentando tanto la generación como el impulso al consumo en euskadi estas son algunas de las iniciativas que ya están en marcha pero desde luego que pretendemos impulsar y dotarlas de mayor recurso a lo largo del próximo año dos mil veinte eskerrik asko

la verdad es que señora tapia tiene razón que no soy muy hábil yo preparando mis interpelaciones y en un día como el de hoy que usted ha tenido tres preguntas y tres interpelaciones pues bueno me comprometo a

para que usted me pueda responder mejor la verdad es cierto

y es cierto que como usted ha dicho dan pasos pero están dando pasos de cara a potenciar la energía centralizada usted se ha referido a la planta de ekian solar es una planta centralizada

para el desarrollo de las energías renovables centralizadas en plantas eólicas

que no está mal o sea ustedes tienen ahí digamos una línea de trabajo y la línea de trabajo que yo le propongo que es la de las energías descentralizadas no es contraria a esa es complementaria yo creo que usted también lo ha dicho en su intervención es complementaria entonces claro yo es cierto que le he sacado tres cuestiones muy concretas a las que quizá

pero yo le quiero incidir en las tres cuestiones por un lado está el hecho de la energía descentralizada como alternativa fíjese yo le voy a sacar las declaraciones de una persona que no es santo de mi devoción

presidente de petronor pero bueno para usted sí que es un santo al que le suele poner bastantes velas y este señor dice en un titular el principal reto de la energía es su democratización y yo creo que este es el reto que tiene no solamente euskadi sino la mayoría de las sociedades industrializadas porque dice el señor lópez atxurra la regulación está muchas veces por detrás de las necesidades sociales

si el mercado evoluciona a una generación descentralizada que además es una herramienta estratégica para la eficiencia y democratización energéticas habrá que adaptarse

desde ya empiece a adaptarse a esta nueva realidad que siga haciendo los proyectos de energía centralizada que crea

pero que de alguna manera le dé un impulso a la energía descentralizada el impulso que merece porque de lo contrario

le he hablado del autoconsumo este es un artículo que apareció en el economista

se pondrán un tejado solar en cinco años y dice en el caso de españa la agencia internacional de la energía augura

de los cuales con las instalaciones distribuidas y de autoconsumo se rozarán los mil megavatios en dos mil veinticuatro eso quiere decir

megavatios que se instalen en el mundo y en españa van a ser de energía eléctrica en autoconsumo de autoconsumo eléctrico entonces ahí ya ve la importancia que tiene no solo mantenernos donde estamos sino incrementar las partidas incrementar el impulso al autoconsumo eléctrico

una cosa menor que son los paneles solares térmicos pero convendrá conmigo después de mi primera intervención que tiene una importancia fundamental de cara a

del consumo de gas o de gasóleo y eso son energías fósiles que contribuyen al cambio climático por último me voy a volver a referir a las comunidades ciudadanas

los agregadores de red y una serie de cuestiones ligadas a las comunidades yo quiero hacerle ver la importancia que tienen

la energía comunitaria ofrece a todos los consumidores una opción incluyente de participación directa en la producción consumo o reparto de energía estas iniciativas de energía comunitaria

energía asequible en vez de dar prioridad a la obtención de beneficios al involucrar directamente consumidores estas iniciativas demuestran su potencial para facilitar la adopción de nuevas tecnologías y patrones de consumo incluidas las redes de distribución inteligentes como ha dicho usted la energía comunitaria puede impulsar la eficiencia energética a nivel doméstico y ayudar a combatir la pobreza energética a través de la reducción del consumo

cuando han sido administradas con éxito tales iniciativas han proporcionado un beneficio económico social y ambiental que va más allá de los simples beneficios derivados de la prestación de servicios energéticos esto le está diciendo la unión europea la comunidad europea y yo le invito a que

quien le diga que se ha preparado mejor o peor la intervención pero o usted no me ha escuchado o yo he estado

que puede ser lo segundo mucho más pero desde luego si estamos hablando de la energía descentralizada o distribuida

como una posibilidad desde luego hay muchos elementos que tenemos que tener en cuenta

de varios en primer lugar si uno va a generar

dentro de su casa con paneles solares evidentemente genera energía y la puede consumir durante el día pero es que por la noche como no hay sol uno tiene que estar además conectado a la red por tanto tenemos que tener unas redes eléctricas inteligentes para que eso pueda ser posible que haya un sistema de almacenamiento y demás

con nuestros centros tecnológicos y nuestras empresas en el poder tener

eléctrica suficientemente inteligente luego para hacer autoconsumo además hacen falta las redes luego le he respondido perfectamente a eso en segundo lugar le he hecho referencia a ejemplos concretos en los que estamos trabajando en producción térmica con renovables

en biomasa en geotermia en hidrotermia luego sí lo estamos haciendo y continuamos le he dicho en presupuestos del eve del próximo año

de autoconsumo y producción descentralizada segundo de los elementos que sí se está teniendo en cuenta las comunidades ciudadanas como consecuencia del decreto que se ha aprobado y hay mayor claridad en cuanto a su implementación dónde estamos trabajando en este momento para que a partir del próximo año dos mil veinte sea posible efectivamente constituir esas comunidades apoyarlas y ponerlas en funcionamiento luego

en que además de la energía centralizada y actuaciones de diferentes características tenemos que trabajar y emprender el camino de la energía descentralizada pero que no es nuevo

estamos de acuerdo que queremos llegar a los objetivos europeos también y por eso tenemos que de acuerdo con ese acuerdo que hemos tenido y valga la redundancia en esta cámara

de la forma más eficiente posible poner en marcha todas y cada una de las actuaciones posibles creo que lo estamos haciendo y que vamos a intensificar nuestra actuación en ese sentido
y creo que le he respondido a todo lo que usted me ha preguntado y quizá en la primera he estado un poco más espesa espero que en esta haya quedado un poco más claro gracias eskerrik asko tapia

buenos días gracias señora presidenta señora consejeros señora consejera con sorpresa

los fondos necesarios para el anticipo del abono de las ayudas de la política agraria común las ayudas pac para el ejercicio dos mil diecinueve un anticipo del setenta por ciento de las ayudas autorizadas por bruselas que según dice la propia convocatoria que ustedes publican pues sería un setenta por ciento de las ayudas de pago básico que son en torno a quince millónes y medio de euros un setenta por ciento del pago verde que son como ocho millónes de euros un setenta por ciento de las ayudas asociadas siete millónes euros un total del régimen simplificado un millón cuatrocientos mil euros la incorporación de los jóvenes un setenta por ciento que son

en torno a treinta y dos millónes aproximadamente lo que tocaría abonar ahora en octubre

y señora consejera estamos preocupados porque usted sabe que precisamente estos adelantos de los pagos de la pac coinciden con el inicio de la campaña de invierno con las siembras cuando se pagan las rentas los gastos se concentran ahora y este adelanto les viene muy bien

aproximadamente por productor y señora consejera nosotros desde el grupo popular insistimos en esta cuestión es verdad que llevamos muchos años desde que esto se puso en marcha

de treinta y dos millónes de euros es muchísimo dinero que es un adelanto a la actividad agraria que evita añadidos que no necesita el sector por lo tanto nosotras señora consejera nosotros le queremos decir cuál es el problema para que este año

a pagar a partir de diciembre señora consejera le pedimos explicaciones sobre esta cuestión

señora lópez de ocariz es cierto que no es la primera vez que hablamos de estos anticipos

este año es un poco especial y ahora le voy a comentar cuál es la razón concreta la intención del gobierno es que se pueda realizar el pago de estas ayudas la primera semana de diciembre y que no se pueda realizar el anticipo de ese pago y se inicie en el periodo

por qué pues el motivo de no poder anticipar este año esas ayudas y usted probablemente lo conoce bien pero se debe a un ataque informático bastante importante

y como consecuencia del mismo se ha afectado a la aplicación informática de la pac y hemos afectado también

puesto que tenemos una aplicación común esto ha incidido

en que el desarrollo de los procesos necesarios para la generación de pagos impidiendo la finalización de los controles que hay que hacer sabe usted perfectamente de admisibilidad previos a poder realizar ese pago anticipado

hubiéramos deseado y que se estaba realizando en otros momentos por tanto dado que es un requisito necesario para poder empezar a realizar el pago adelantado este año va a ser imposible realizarlo porque no cumplimos lo requisitos necesarios para realizarlo se realizará cuanto antes y desde luego

de diciembre de este año dos mil diecinueve eskerrik asko tapia

efectivamente señora consejera en dos mil diecisiete le preguntábamos por esta cuestión por estos abonos y nos decía ahora sí ahora sí ya estamos en condiciones de contar

común dotada de los más óptimos mecanismos de eficiencia posibles

ha sido posible el abono de los adelantos pac quiero recordar que también fueron posibles estos adelantos

con estos supermecanismos de la mayor eficiencia solo por recordar nos decía la señora consejera en dos mil diecisiete que había asumido el gobierno vasco junto con las diputaciones el desafío de contar con una estructura informática propia que asuma toda la organización

como del gobierno y señora consejera esta herramienta informática que

la realidad es que lo que parecía que se presentaba como un sinónimo de eficacia lo propio está resultando

cuatro años que no tuvieron los anticipos pac esperando esta herramienta cuando la tenemos explota contamos con el basque

organización que promueve la ciberseguridad en euskadi tampoco esto nos ha salvado

tenemos lo propio pero no seguro señora consejera nosotros apostamos por lo seguro aunque no sea propio me ha entendido eskerrik asko

mezclemos seguridad absoluta con una herramienta que puede ser más o menos efectiva

que perfectamente funciona en condiciones normales si usted me demuestra que hay un solo sistema informático uno solo en todo el mundo que sea cien por ciento seguro se lo compro pero en este momento nadie ninguna empresa ningún particular ninguna administración está cien por ciento segura ante ataques determinados

suficientes todas las administraciones tenemos empresas especialistas en colaborar y en ayudar para prevenir en la medida de lo posible y poner medidas actuar de una forma rápida pero desde luego no existe una sola organización ni un solo sistema que sea cien por ciento seguro eso no significa y no hay que mezclarlo en ningún caso

muchísimo mejor para poder atender a esos pagos en condiciones normales ahora bien dada la situación que se ha producido este año no es consecuencia de la ineficiencia

comentaba previamente y se lo reitero la primera semana de diciembre se realizarán esos pagos de la forma más acelerada posible eskerrik asko eskerrik asko

zurea da hitza bai eskerrik asko las dificultades de la juventud para emanciparse familias que no pueden afrontar

por no poder pagar los alquileres este es uno de los mayores problemas que afronta la sociedad

ante esta situación cómo valora usted los últimos datos relativos a las rentas medias de alquiler eskerrik asko

gracias presidenta señor martínez creo que

tomar decisiones a partir de lo que indican esos datos ya sea adaptando las políticas que ya estaban en marcha o tomando nuevas medidas los resultados de la estadística de mercado de la vivienda de euskadi nos previenen disponer por primera vez

fidedigna del coste de los contratos de alquiler no estamos hablando de estimaciones o de precios de oferta sino de rentas reales que pagan cada mes los arrendatarios de viviendas colectivas en los municipios vascos porque los datos proceden como sabe

depositados desde dos mil dieciséis los datos en este sentido son datos objetivos y son los que son

es sustancialmente más bajo que el que resultaba de los indicadores de los portales inmobiliarios

para paliar la ausencia de una información fehaciente pero también nos dice que su importe es gravoso

sobre todo en las capitales y muy especialmente en donostia y en bilbao eskerrik asko arriola jauna martínez zatón zurea da hitza

señor consejero usted lo sabe mejor que yo según sus propios datos el alquiler en euskadi ha subido ciento setenta y ocho coma cincuenta euros en los últimos años

conocemos ese nuevo índice que ha sacado el gobierno esa renta mensual efectiva de seiscientos cincuenta y uno euros donosti ochocientos cincuenta y nueve bilbao setecientos veinticuatro y gasteiz quinientos noventa y tres ahora bien solo hace falta echar un vistazo rápido usted decía que eso era real le voy a dar otra el principal portal inmobiliario que en la que viven en la que se miran los alquileres en euskadi por ejemplo donosti según el alquiler que cifra en su índice

que dice el gobierno egia setecientos cincuenta euros cincuenta metros anoeta ochocientos cincuenta euros cuarenta y nueve metros o casco viejo

metros o tenemos el caso de bilbao veintiséis viviendas según el precio del índice que usted ha dicho las tenemos aquí veintiseis viviendas en este mapa ahí se ven los puntos bilbao la vieja setecientos euros cuarenta metros cuadrados o san francisco seiscientos euros cuarenta

paradójico que es el de gasteiz este todavía es más rápido ninguno ninguno la búsqueda no ha dado ningún resultado según el precio que dice usted que dice ese índice

es cierto pero explíquenos ahora cómo concordamos ese dato de la renta mensual efectiva con esta fotografía que creo que es más real de los vascos y de las vascas cuando van a buscar un alquiler en el mercado libre sabe

mientras ustedes nos intentan convencer de que no es para tanto la burbuja del alquiler hay miles de personas hay miles de jóvenes que no pueden acceder a una

la vivienda señor arriola se lo llevo diciendo aquí tres años si a usted y su departamento realmente le preocupase la situación que sufren miles de personas en euskadi

tomando medidas ustedes el partido nacionalista vasco y el partido socialista de euskadi para castigar fiscalmente

de la vivienda pública y no como están haciendo ahora edificando todavía con dinero público el doble de viviendas para comprar que para alquiler estarían haciendo

asequible y no cuestionarían como hizo usted hace unos días que es necesario limitar por ley los precios de alquiler y que ya que sus propuestas son más viables y efectivas aquí tenemos la muestra de lo viables y efectivas que son

porque no sé si a usted le preocupa o no le preocupa pero yo creo que su departamento tiene una estrategia comunicativa perfecta pero que le falta la misma efectividad para hacer las políticas públicas

de esta mañana feliz dos mil quince señor arriola año en el que se aprobó la ley

cuatro años después de la aprobación de dicha ley es hora de cumplir de una vez con la ley y de poner en marcha todos

señor martínez qué quiere que le diga yo no me invento nada

estadística una información objetiva que se basa en una realidad que nos empeñemos o no está ahí que es el análisis de cuarenta y seis mil contratos de alquiler

donde se encuentran las fianzas que hacen referencia

y eso es la realidad si no queremos verla

fin usted me dirá una realidad que lo he dicho tiene que ver

la oferta es una cosa y la realidad de los precios reales que se están pagando en euskadi es otra y esa es la que está registrada

por parte de las delegaciones de vivienda y disponer

no resuelve el problema de la carestía de los alquileres por supuesto una carestía que se produce por partida doble por una parte porque hay poca oferta

son elevados y están más allá de la capacidad de una parte importante de la ciudadanía lo he reconocido

efectiva sea notablemente inferior a la que se venía estimando no es ningún consuelo pero conocerla supone una gran ayuda para afinar nuestras políticas de vivienda en alquiler reconocer

ni ponerse paños calientes al contrario nos da la base para modular mejor nuestros programas y por ejemplo parece que no estábamos tan desencaminados cuando ajustamos los precios máximos del programa bizigune

o revisamos el programa asap y tampoco en la revisión que estamos haciendo en las condiciones del programa gaztelagun para facilitar

esta información sobre las rentas medias nos va a permitir afinar la articulación de la propuesta fiscal para fomentar

para tomar decisiones para articular medidas para hacer propuestas para ajustar programas y para intentar acertar
en la medida de lo posible muchas gracias eskerrik asko

hace escasas semanas estaba desayunando en casa y ojeando la prensa

por parte de mi familia me gusta cocinar y es una tarea que compartimos la mayoría de lo que estamos aquí

leo el titular en un medio de gran tirada en el país vasco y

éxito de titular porque me lance rápidamente a ver el desarrollo de esa noticia porque me pico mucho la curiosidad

ese titular corresponde a las declaraciones de un alto responsable de su departamento que dice que están elaborando

los espacios mínimos y las medidas que deben tener las viviendas en un futuro en el país vasco dije bien esto es parte de su competencia está bien que trabajen en esas cosas

y que además lo están haciendo siguiendo desde el foco de la perspectiva

es una obligación legal y es parte del compromiso que reiteradamente ha puesto en voz alta su gobierno

y veo que han decidido inicialmente en ese borrador todo esto son palabras del responsable de su departamento que hay que eliminar los espacios ciegos las zonas peligrosas para evitar los ataques a las mujeres dije yo bueno está bien sí siempre también será a los niños

pero lo que más me llama la atención es que dice que han colaborado se han puesto a colaborar con expertos en igualdad

entonces a mí eso ya me pareció un poquito rancio trasnochado viejo mal había tufillo

esas declaraciones de su portavoz esa es la medida estrella de ese borrador de decreto porque si esa es la medida estrella miedo me da qué es lo que puedan proponer ustedes para el aumento de la natalidad cómo van a ser los espacios de los dormitorios pero mi pregunta

comparte usted esas declaraciones y esa idea que ha trasladado un alto responsable
de su departamento sobre lo que tienen que ser las viviendas de futuro en euskadi gracias eskerrik asko ruiz de arbulo jauna

gracias señora presidenta señor ruiz de arbulo

no lo voy a decir pero igual más del ochenta por ciento de la comida que se hace en mi casa he cocinado yo igual más pero bueno no es el caso

seria y sabe que para informarse claramente de una cuestión no es bueno quedarse en la espuma de algunas noticias sino ir al fondo a lo que realmente han dicho

tanto el director como el viceconsejero de vivienda y a lo que dice el propio borrador con su exposición de motivos y sus anexos he escuchado las intervenciones públicas de los cargos de nuestro departamento y tengo que decirle que sus declaraciones se atienen

al margen de algunas interpretaciones sesgadas ligeras y frívolas que se han hecho

de interioristas diseñadores y sociólogos urbanos

han sido por regla general muy positivas con orientación y contenidos del borrador

por cierto lo que ha ocurrido es que se hable como nunca antes en nuestro país sobre cómo debe ser una vivienda lo cual

algo positivo eskerrik asko arriola jauna ruiz de arbulo

señor arriola yo es que no he tenido oportunidad de conocer el desarrollo de ese borrador y es que estas declaraciones no provienen precisamente de un trabajo de investigación de los periodistas sino que

no que esté ya hecho no es que se vaya a traer aquí el decreto no es que se vaya a publicar o se vaya a aprobar

ustedes abandonan a parte de los distintos modelos de familia que tenemos en nuestra comunidad y además está muy lejos de la realidad de las parejas y de las familias que viven en euskadi y yo no es que quiera ser frívolo porque si hubiera querido ser frívolo señor consejero

de comentarios de pitorreo que hay en las redes sociales o muchas otras declaraciones que se han hecho en diferentes medios de comunicación por expertos en la materia que el borrador sea necesario yo no lo pongo en duda

como de costumbre en la primera intervención es cuál es su opinión sobre ese tipo de declaraciones sobre esa línea argumental

el objetivo es que se hable de su borrador eso ya lo han conseguido quizá como nos decía su portavoz el otro día lo importante en política son los gestos y no es importante ejecutar las partidas presupuestarias del diez por ciento del presupuesto de su departamento sino

esa posición sobre un problema concreto del gobierno ante
esa situación le insisto en mi pregunta y a ver si esta vez tengo suerte está usted de acuerdo con esa línea argumental o no está de acuerdo eskerrik asko ruiz de arbulo jauna arriola jauna zurea da hitza

señor ruiz de arbulo le he contestado en mi primera intervención no sé si me ha escuchado está grabado insisto para criticar o incluso para opinar

informarse antes se ha centrado mucho la atención como si fuera una gran novedad

siete metros pues resulta que este es el tamaño que ya se exige en euskadi para las viviendas de protección oficial mire usted es la misma dimensión que figura en las ordenanzas

de bilbao y de otras muchas localidades de euskadi lo que pretende el decreto que es de habitabilidad y normas de diseño de la vivienda es unificar una norma dispersa y alinearla con los contenidos del espíritu de la ley de vivienda del dos mil quince y por supuesto incorpora

eficiencia energética versatilidad y adaptabilidad exigibles hoy en día a un espacio en el que discurre gran parte de nuestra vida

también se ha introducido la perspectiva de género como se ha aplicado en las directrices de ordenación del territorio y como reclama la ley de igualdad

no sé pero sucede que si no miras algunas cosas con ese enfoque con esa perspectiva

al diseñar el portal de un edificio los pasillos u otras zonas de uso común que hay que evitar recovecos o ángulos ciegos que propicien situaciones de inseguridad especialmente

quienes han elaborado el proyecto no son ingenuos ni talibanes

que por dar mayor tamaño a una cocina se va a resolver mágicamente

sino de favorecer que en ese espacio pueda haber físicamente más de una persona cocinando comiendo fregando

que todavía no ha pasado siquiera por el proceso de información pública y alegaciones las personas que han vertido descalificaciones de oídas en modo

de leerse sus contenidos y de proponer unas modificaciones que consideren oportunas

dagoelako señor consejera mi pregunta es la siguiente ante la más que evidente desaceleración de la economía

real del gasto y la inversión pública van a poner para ello en marcha todas las herramientas

eta horren inguruan egiten ari den politikak estrategikotzat jotzen ditu retomando las palabras exactas del viceconsejero con las que por cierto estoy completamente de acuerdo

de todo el marco de estabilidad y esta es una tarea ardua que requiere tiempo por lo que sería

al mismo tiempo algún instrumento europeo de estabilización de suficiente tamaño por ello quiero aprovechar esta pregunta para volver a exponer nuestra posición en relación

donde ya se están escuchando voces que abogan por una clara flexibilización

a un retraimiento de las políticas de gasto y sobre todo de la inversión no lo digo yo lo dice

donde se propone reforzar los incentivos a las inversiones que pueden estimular el crecimiento aprovechando además el escenario de bajos tipos de interés

dentro de los márgenes en los que puede actuar como sabe usted hemos aprovechado a fondo estos dos últimos años con paquetes de cincuenta y cuatro y noventa y ocho millónes en dos mil dieciocho y dos mil diecinueve respectivamente para impulsar las inversiones sostenibles pero lo hemos hecho porque hemos cumplido las normas de estabilidad financiera y sostenibilidad financiera y en este modo de actuar es algo en lo que usted y yo

a tenor de la formulación de la proposición no de ley presentada el pasado mes de septiembre de derogar la ley orgánica de estabilidad presupuestaria y yo sin embargo abogo por su reforma para proceder a la flexibilización de sus normas imperativas

aurka agertzen direnak mire un ejemplo el instituto de investigación económica de berlín que dice aferrarse al déficit cero como un fin en sí mismo sería un error fundamental ahorrar

y eso mismo es lo que desde eh bildu venimos reclamando porque la recesión está aquí y hay que combatirla tenemos medios para ello señor consejero tenemos medios para ello utilicémoslos utilícenlos

mañana puede ser tarde para hacerlo porque lo que nos impide avanzar en las políticas fiscales son las normas que el estado insisto el estado y ustedes disponen son la ley de estabilidad presupuestaria como usted bien ha dicho la regla del gasto el déficit cero porque sí y todas las limitaciones que el estado impone mientras ellos el estado no cumple sus propias limitaciones

tresnak dira eta ez dira helburuak y las tenemos que utilizar en toda su potencialidad en beneficio de la sociedad vasca

exijamos y ejerzamos la posibilidad de utilizar todas las herramientas disponibles para impulsar el gasto y la inversión pública en beneficio de la ciudadanía vasca en beneficio del futuro de nuestro país porque los corsés que nos impone el estado

invariables no pueden ser irrompibles pongamos en práctica nuestra autonomía financiera esa tan alabada autonomía financiera pongámosla y exijamos al estado las herramientas que nuestra economía tiene porque las tiene para responder con solvencia a lo que viene porque lamentarse no basta e insisto mañana puede ser tarde señor consejero hagamos ese camino entre todos hagamos ese camino

hurbiltzeko bide bat topatzen dugunean benetan y como le decía en la primera intervención

esto es la bondad de apostar por cierta reactivación del gasto público

y estabilidad financiera y abogando por una lectura menos estajanovista de la regla de gasto

puede resultar y de hecho resulta como usted ya ha dicho innecesariamente encorsetadora

el tema que nos trae hoy aquí es un tema de largo recorrido es un tema sobre el que hemos insistido

y se ha debatido en este parlamento bien en la sesión plenaria bien en las comisiones de educación multitud de veces por tanto permítanme que haga que explique los antecedentes más recientes no me voy a remontar más miren

ahora hace algo más de un año en esta sesión plenaria se aprobó

no de ley sobre el tema del transporte de los menores e incluso con un punto sobre los mayores de dieciséis

es un problema que ha surgido una y otra vez y en el punto

se decía directamente se instaba al gobierno a que inicie la colaboración interinstitucional para garantizar en el curso escolar dos mil diecinueve dos mil veinte el transporte del alumnado de entornos rurales con edades comprendidas entre dieciséis y dieciocho años tanto de bachillerato como de formación profesional

educativos por qué porque claro sabemos que la obligación del departamento acaba cuando se finaliza

obligatoria pero claro qué joven de nuestro país qué chica o chico puede lanzarse al mercado laboral con unas mínimas garantías de empleabilidad y de éxito sencillamente

una educación posterior es necesaria bien sea en formación profesional bien sea en bachillerato para luego abrir otros caminos y tenemos que tener en cuenta que estos jóvenes tienen edades

son menores de dieciocho años por lo tanto aunque la obligación termine para el departamento de educación en la educación secundaria por eso le instábamos a que por no ser su competencia plena colaborara con las diputaciones que tienen competencias en transportes para organizar un sistema para que se solucionara

la problemática de estos jóvenes de dieciséis a dieciocho años

porque hay satisfacciones hay que reconocerlo que el día dieciocho de febrero

el departamento de educación firmo con la diputación foral de gipuzkoa un convenio sobre el tema es decir cumplió

este convenio se titula convenio de colaboración entre la administración general de la comunidad autónoma de euskadi y la diputación foral de bizkaia para prestación del servicio de transporte escolar

post obligatorias una alegría yo personalmente siempre le pido al departamento que me dé alegrías y esto es una alegría pero claro décimos con bizkaia está muy bien pero

la provincia o el territorio que tiene una problemática más importante en este tema y la verdad nosotros creemos que no

pero tiene multitud de municipios que por el número de habitantes en ellos tienen ya la obligación de tener

cosa que no ocurre en gipuzkoa cosa que no ocurre en álava entonces vamos a ver es una alegría porque hemos conseguido

en nuestra opinión difícil lo menos oneroso que es llegar a un convenio con una diputación que tiene ya muchos municipios

propio o que viven muy cerca de otros que tienen ese trasporte propio he mirado hace un rato la lista de municipios

hay un buen numero pues no sé si me han salido catorce

nuestra interpelación es para saber qué se está haciendo qué se planifica respecto de gipuzkoa

miren dicen que gipuzkoa es el territorio más pequeño de euskadi yo siempre digo que eso no es cierto el problema de gipuzkoa es que está arrugado

que es muy montañoso es decir es un mapa para ir de a

tiene uno que subir hasta una cumbre y volver a bajar pues resulta que si lo extendiéramos sería

gipuzkoa no es el territorio más pequeño es un territorio

más complicados y más difíciles estoy segura que todos los guipuzcoanos aquí estarán de acuerdo conmigo

entonces son cuatro valles cuatro valles el territorio guipuzcoano son cuatro valles rodeados de montañas bueno y luego vamos

nuestro territorio más grande porque está aplastado mayormente entonces nuestro territorio más grande pero con la menor población de trescientos y pico mil habitantes el setenta y cinco por ciento vive en vitoria

porque probablemente porque no son los valles de gipuzkoa el agua fue una de las primeras fuerzas que impulsó la industrialización y la empresa

ha tenido una economía agraria y estoy hablando pues desde luego hasta mitad mediado del siglo veinte seguro seguro

porque es importante arraigar a las personas en su territorio pues es importante por los siguientes motivos las personas en su territorio

la economía tradicional mantienen la economía tradicional que es el sector primario y que desde luego ahora con un mundo globalizado

del resto de las economías mantienen las culturas locales mantienen la cultura local cada municipio cada

idiosincrasia su forma de expresarse es más a veces se acentúan porque se acentúan en contraste con la cuadrilla de al lado

cada cuadrilla cada territorio cada municipio tiene un patrimonio un patrimonio histórico

que con la despoblación se perderá el románico de álava no lo tenemos en los otros territorios no lo tenemos y qué va a pasar con ese románica e incluso arquitectura civil gótica

territorios y con la despoblación

y qué es necesario para mantener a las personas en su municipio pues es necesario primero en estos días que sabemos por una intervención anterior que sí se está potenciando pero para las empresas para no sé qué no para los ciudadanos

servicios básicos de educación de sanidad y sobre todo buenos transportes públicos en este país en euskadi yo no sé por qué renunciamos en gran medida al ferrocarril

a hacer carreteras pero antes había unos ferrocarriles que llegaban prácticamente a todos los pueblos mi opinión personal es que debiéramos recuperar todos aquellos

pero vale nos hemos volcado en las carreteras menos sostenible más contaminante etcétera etcétera pero por favor

porque si no no vamos a poder arraigar a las personas en su territorio muchas gracias lo que le interpelo a la consejera

qué va a hacer respecto de los convenios con las otras diputaciones

tal y como se trasladó en la comparecencia del diecisiete de diciembre de dos mil dieciocho basándonos en la experiencia acumulada

creada en el artículo doce del decreto vigente desde el departamento de educación hemos entendido que la prestación del servicio de transporte escolar requiere de una nueva regulación todo ello en aras a mejorar y garantizar a todo el alumnado el acceso al servicio complementario de transporte escolar factor que condiciona

con este objetivo principal este departamento está elaborando y tramitando un proyecto de decreto para modificar la actual redacción del decreto

de los centros docentes públicos no universitarios de la comunidad autónoma del país vasco en aras a incorporar la formación profesional básica y el alumnado de dos años esta tramitación se encuentra en la fase final tras recibir esta misma semana el informe de la comisión jurídica asesora

el departamento ha seguido trabajando y todas las situaciones de excepcionalidad han sido llevadas a la comisión de seguimiento con el objetivo de dar respuesta a las necesidades supuestos y casuísticas

concretamente en relación con las autorizaciones excepcionales que no cumplen el requisito de la distancia señalar que se han atendido todas las solicitudes recibidas y que responden mayormente a una doble casuística

que requieren un tratamiento diferenciado y trayectos que por cuestiones relacionadas con la urbanización iluminación etcétera presentan especial dificultad en un trayecto a pie

adicionalmente en aras a facilitar la gestión e informar a las familias y tal y como se trasladó en la

dicha comisión de seguimiento desde principios del presente ejercicio dos mil diecinueve ha resuelto publicar todas aquellas excepcionalidades en la página web

se ordenó la publicación de la relación de autorizaciones excepcionales ratificadas en la comisión de seguimiento de transporte escolar de fecha de veintidós de enero de dos mil diecinueve

actualmente vigente por territorio histórico están disponibles

es ver que las preparamos en las mismas fuentes entonces siendo yo la única

toda la ayuda de mi grupo pero siendo especialmente responsable pues ver que uso las mismas fuentes que usa todo el departamento me llena de satisfacción

vamos a ver pero si ya le he dicho que yo me alegro mucho mucho mucho de que se haya firmado

y que ha sido una alegría pero el problema es que nos quedan las otras dos diputaciones le tomo la palabra de que en breve plazo se resolverán pero mire el nuevo decreto y todo lo que hayamos y las mejores intenciones no solventan problemas concretos y perdone mire tengo aquí un documento firmado por el señor presidente de la cuadrilla de añana

de hace un mes y está hablando del transporte en edades obligatorias

no en edades obligatorias sabe lo que nos dice que verdaderamente como ustedes dicen

estudiado cada caso particular y entonces tenía una línea que era un autobús de cincuenta y nueve plazas partían de ribabellosa a las ocho quince y otra línea que

y dice que después de dos semanas de funcionamiento y estamos hablando de este curso los usuarios de la segunda línea tardan en acudir al centro un tiempo superior a la hora una hora en el transporte escolar el plazo máximo que fija el mismo departamento entonces se desdobla una línea que es lo que ustedes yo

hemos estudiado todas las casuísticas concretas y hemos aplicado

porque nos vuelve a explicar el presidente de la cuadrilla de añana que los viajes duran

para niños porque aquí se están refiriendo a los niños que están en edades todavía de enseñanza obligatoria es más el pobre hombre que es un hombre que se ve que intenta respetar todo y tal

y dice literalmente con la finalidad de plantear alternativas hemos contactado con un taxista de la comarca

este planteamiento haría viable que los transportados de ribabellosa

fueran directos a nanclares de la oca y que los transportados de la línea dos

permitiendo reducir los tiempos a menos de cuarenta minutos mire

estoy segura de que han cogido todas las casuísticas las han intentado resolver pero es que aquí tenemos al presidente de la cuadrilla de añana que el veintiuno de septiembre nos dice

y el pobre hombre hasta plantea alternativas discurre es decir no es una persona sencillamente que se queja

entonces consejera sabiendo que no es un tema fácil nuestro grupo de verdad le anima y le insta con amabilidad

básico un niño de la enseñanza obligatoria no puede pasarse bath quince min en el autobús para llegar al colegio

que esos se montan en el autobús cuando quedan plazas libres

este problema y ya lo último que le voy a decir ya sé que ustedes se esforzarán pero va tan lento tan lento tantas propuestas que ha hecho este grupo que tenemos que agradecer que algunas de ellas se han incorporado a la labor del departamento

y la vida de los niños varía tan rápidamente

se suele decir que las cosas de palacio van despacio pues las cosas del departamento del gobierno vasco van lento lento

la variabilidad en muy poco tiempo de la vida de niños y adolescentes porque eso es verdaderamente primordial

he comentado en mi intervención anterior somos conscientes de la necesidad de avanzar incorporando nuevas medidas y lo estamos haciendo y como hemos comentado también la comisión de seguimiento sigue analizando todas las casuísticas que se le van planteando y buscando soluciones

pues bueno pues me imagino que también habrá sido analizada y si no se analizará de todas formas el motivo de la interpelación era el transporte de las enseñanzas postobligatorias en los otros dos territorios tras haber firmado el acuerdo

y creo que es interesante conocer el tema en su magnitud para tener un poco más de información

su contexto como he destacado en la intervención anterior

a través de quinientos cuarenta y dos itinerarios con absoluta garantía de seguridad y sin ninguna incidencia según el convenio

actualmente pueden acogerse al servicio del transporte escolar organizado por el departamento de educación el alumnado de enseñanzas postobligatorias matriculado en institutos públicos y residentes en los municipios de ispaster mendexa amoroto y gizaburuaga cumpliendo con dos premisas

y que acudan al centro educativo que les corresponde por el itinerario establecido en este caso

en este curso escolar por cuantificar un poco el tema en el diecinueve barra veinte hay un total de veintisiete alumnos y alumnas

centro que les corresponde por itinerario es decir de ispaster nueve alumnos y alumnas de mendexa cinco alumnos y alumnas

elkarlanari buruz barrio jauna zurea da hitza sí muchas gracias presidenta buenos días

consejera consejeros buenos días de nuevo bien esta es una pregunta en relación con una información que se hizo pública hace algo más de un mes la universidad del país vasco

interdisciplinar de estudios jurídicos ikasmirak juntamente con la red de apoyo a presos de eta

y han establecido una estrategia propia suya conjunta para qué

de las autoridades españolas eso de sare no nos extraña pero de la upv ya sí ante el consejo de derechos humanos de la

y en un informe de apenas ocho páginas de contenido

siempre en relación con las estrategias de la izquierda abertzale y del apoyo a los presos de eta pues graves denuncias al gobierno de españa acusados de incumplimientos del cumplimiento de la ley

y en ese sentido nosotros lo que queremos es su valoración nosotros pensamos que la política penitenciaria se cumple con respecto

y a las resoluciones de los tribunales pero cómo valora esa colaboración de la universidad del país vasco que es un medio público
una instancia de parte para descalificar al estado de derecho muchas gracias eskerrik asko barrio jauna erantzuteko

la utilización de la upv para atacar de esa manera al estado de derecho y a las instituciones del estado yo

o sea que yo le ruego que traslade como consejera de universidades que es por lo menos nuestro descontento

el hecho de que no entendemos ese papel de la upv como facilitador de la izquierda abertzale es que le coloca más bien con este tipo

más cerca de la izquierda abertzale a la upv que de las víctimas del terrorismo es que la upv no es un abogado

instrumento público un medio público un servicio público y en este momento la upv

contra el estado del nacionalismo también

en ese sentido con algunas actuaciones de estas características una estrategia

nuestras políticas públicas una obsesión por utilizar los medios públicos para atacar desde luego las instituciones del estado y sus normas y ahora le ha tocado también a la upv es una curiosa alianza con sare con la red

para criticar al estado español una vez más además el informe es que tiene errores

y es que además un informe de esas características debiera de valorar los pronunciamientos del tribunal europeo de los derechos humanos en diferentes momentos y el más reciente el veintiocho de mayo de dos mil diecinueve el informe de la upv con sare es de mayo y el tribunal europeo de los derechos humanos ha declarado inadmisible un recurso presentado recientemente

y ya entiende que la política de dispersión está justificada y amparada por la ley y no vulneró los derechos fundamentales eso no
analiza la sentencia o sea que falta de proporcionalidad y objetividad por parte de la upv eskerrik asko barrio jauna uriarte anderea zurea da hitza

la upv ehu el centro interdisciplinar de estudios jurídicos ikasmirak está formado por un conjunto de investigadores e investigadoras

y al derecho penitenciario de la misma forma que ha organizado otras actividades sobre personas en situación de vulnerabilidad extranjería minorías etcétera el estudio sobre los derechos de las personas presas y otros colectivos en situación vulnerable los contratos

así como la divulgación de los resultados de tales investigaciones entra dentro del marco de la normalidad de la actividad universitaria insisto toda esta labor de investigación y estudio entra dentro del marco de la normalidad de la actividad universitaria y no podemos olvidar que de acuerdo con los estatutos de la upv

la upv ehu goza de plena autonomía y está dotada de personalidad y capacidad jurídica

está trabajando en aspectos que pudieran ayudar a superar este conflicto laboral como usted ya sabe porque se lo hemos trasladado por escrito en respuesta a una pregunta similar ha realizado hoy el departamento se ha reunido tanto con la patronal como con los sindicatos de los centros concertados de iniciativa social siendo más de treinta los encuentros mantenidos no uno

así como de rejuvenecimiento de plantilla favoreciendo el contrato relevo

a que las partes se acojan a la posibilidad de intermediación que puede instarse por cualquiera de las partes afectadas en aras a facilitar una vía de encuentro

del dos coma veinticinco por ciento aplicado tanto al profesorado de la enseñanza pública como de los centros concertados que ha supuesto un incremento de veintisiete coma cinco millónes de euros al que hay que sumarle el cero coma veinticinco por ciento recientemente acordado que se aplica ahora en las nóminas se ha dado la equiparación salarial del profesorado de secundaria obligatoria

que ha supuesto dos coma cinco millónes de euros más además de una propuesta firme que aborda la posibilidad de recolocación del personal que se ve afectado por la disminución de aulas

estos son hechos son acciones que el gobierno ha ido poniendo en marcha y planteando

ez da egia ez nahastu gizartea ez nahastu hezkuntza komunitatea hemos puesto en marcha hemos puesto encima de la mesa propuestas que deben ser valoradas positivamente con el objetivo de facilitar

y a la búsqueda de posibles soluciones propuestas y hechos señora ubera me gustaría reiterar como he dicho en otras ocasiones que sin duda se trata de una situación compleja

especialmente las patronales educativas y los sindicatos como partes enfrentadas en este conflicto laboral insisto el gobierno vasco el departamento de educación ha hecho está haciendo y va a hacer todo lo posible para ayudar a encauzar este conflicto laboral en este sentido ante la

que estaríamos dispuestos a que en caso de que solicitara la mediación de las partes en conflicto a estar presentes

ha solicitado formalmente al consejo de relaciones laborales que inicie el procedimiento de mediación

entre las dos partes si nuestra presencia facilita que las partes se sienten a negociar ahí estaremos desde nuestra responsabilidad vamos a colaborar a dar salida a este conflicto de una vez por todas que lo único que está haciendo es perjudicar

sailburuak compañeros y compañeras parlamentarias es un problema sencillo que vengo a traer aquí es un problema de la vida cotidiana la oportunidad de un barrio de bilbao de trece mil habitantes que es iralabarri de disponer de un centro de salud que se les prometió

es una pregunta que hace seis meses ya plantea la consejera y que obviamente les hubiese gustado en el centenario del barrio que se celebró hace

pero ha habido distintos problemas que han sido ya comentados y que me gustaría sacarlos otra vez a relucir

algún comentario esta es la pregunta cuándo podemos inaugurar el centro de salud de irala

para algunas de las discusiones que tenemos aquí eskerrik asko

sailburuak uria jauna en relación a los tiempos que usted estima entre cinco y ocho años entre la decisión de inversión en centros sanitarios y el inicio de obras quiero destacar que en osakidetza contamos con miles de edificios en los que ofrecemos atención sanitaria estas infraestructuras forman parte de las osi redes de salud mental

y otras exclusivamente en atención primaria contamos con más de trescientos treinta centros de salud y ambulatorios distribuidos por los tres territorios históricos por lo que sin miedo a equivocarnos la accesibilidad

y por ello seguimos incorporando nuevos centros o adaptando los existentes a las necesidades asistenciales esta dotación de infraestructuras evidencia que la inversión del gobierno vasco a lo largo de los treinta y seis años de historia de osakidetza ha sido continuada y constante sí

es importante y está recogido también en nuestra estrategia de atención primaria estamos poniendo en marcha treinta y cinco medidas y está el mejorar los espacios asistenciales y la accesibilidad a nuestros centros de salud para dar respuesta a las necesidades de atención primaria

los nuevos centros de salud o las reformas de estos se deben adaptar a las necesidades específicas de cada comunidad a la que van a proveer de servicio de salud y a sus planes funcionales adicionalmente conllevan cambios organizativos

para distribución de los cupos así como de los propios profesionales respecto a este nuevo centro de salud de irala que a usted

me es muy grato confirmarle que tenemos el compromiso firme y que se está trabajando y avanzando y que tenemos fecha de hecho le diré

de salud de irala en este ejercicio dos mil diecinueve y que la

terminada para el verano de dos mil veinte eskerrik asko eskerrik asko murga

bakartxo tejeria señora consejera le agradezco la información conocíamos que se ha licitado

la licitación para la habilitación de obras en las plantas del edificio harino panadera que es donde el ayuntamiento de bilbao en febrero del dos mil diecinueve cedió los locales

finalizase la legislatura podríamos inaugurar el centro de salud

yo estoy hablando de otra cosa estoy hablando de la importancia de cumplir compromisos quiero decir

exconsejero rafa bengoa y el exalcalde de bilbao

hace nueve años con un nuevo centro pues que no se comprometan

no lo vamos a hacer que la administración pública

sabemos que en julio se ha licitado las obras para la remodelación del centro de salud de irala pues que se explique y en el ambulatorio

aproximadamente en ocho meses dispondremos del nuevo centro de salud en irala

no planteamos otra cosa que transparencia e información que la gente no se canse

desplazar los funcionarios municipales del equipo de salud pública que están allí no saben fechas

funcionarios y profesionales a dónde van habrá que llamar a la concejal

yo me refiero no a su buena voluntad no a la buena voluntad del ayuntamiento de bilbao sino a un cansancio generalizado que muchos vecinos y vecinas tienen

desde que discutimos este asunto han pasado seis meses y la licitación ha sido en julio todavía no se ha adjudicado el pliego de contratación en la mesa se presentó en mayo todavía no se ha adjudicado ninguna casa siete meses de obras estamos pensando en mayo aproximadamente usted dice ahora en verano no pasa nada sabemos que hay infraestructuras que necesitamos para la reforma de atención primaria porque van con los dos pies

programas e infraestructuras suficientes ojalá después de cien años

de un centro de salud propio donde pueda desarrollar los ya exitosos programas de actividad comunitaria
que se desarrollan en colaboración con el ayuntamiento de bilbao eskerrik asko eskerrik asko uria jauna

osakidetza identificó el local que se adaptaba mejor a sus necesidades hace menos de un año

el expediente de contratación de las obras de habilitación está tramitado y la firma de su contrato correspondiente está prevista sobre mediados de noviembre

por el ayuntamiento y en breve será definitivamente concedida por otra parte los movimientos de personas que actualmente trabajan

están analizados y coordinados entre las instituciones implicadas lanbide ayuntamiento de bilbao

ya están identificadas las reubicaciones también contamos con el plan funcional y la reorganización de los cupos y de los profesionales

se han dado ya un gran número de pasos y es cierto que las cosas llevan su tiempo

y estarán finalizadas para mediados del próximo año bitartean beste esparru batzuetan ere lehen arreta indartzen jarraituko dugu

señora consejera señor consejero muy buenos días le ahorraré

y sus circunstancias entendiendo que estamos hablando de un edificio sobre el que ya se ha debatido también en esta cámara pero

de este de este magnífico edificio y si cabe algún apunte histórico que pueda

como usted sabe y no todo el mundo conoce el edificio del bellas artes es un edificio singular

también por su contenido fue el primer cinematógrafo que se construyó en españa y también por la fecha de su construcción que data en torno a mil novecientos catorce y también es uno últimos

a la primera guerra mundial en el conjunto de europa por lo tanto es un edificio que tiene un valor interesante por su historia por su origen arquitectónicamente es un edificio aunque sobre esto puede haber matices y discusiones es un edificio con un valor arquitectónico y por su configuración en la trama urbana y por su posición

de interés y de valor tal es así que en el año dos mil catorce el propio gobierno vasco manifestó que el bellas artes y esto son palabras textuales era portador de valores culturales que justificaban

y de esta manera no se quedó solo una mera declaración por parte del gobierno vasco sino que en el año dos mil quince fue declarado bien de interés cultural es cierto que esta calificación esta protección de bien de interés cultural tan solo duro dos años porque el gobierno vasco se retractó

elimino la protección definitiva que dos años antes le había otorgado al edificio del bellas artes llegamos a la actualidad hace pocos

está asociado a la unesco emite una alarma internacional sobre la situación del edificio y sobre la necesidad de incrementar la protección con la que cuenta este edificio que básicamente es el

la acción que pueda desarrollar el gobierno vasco no es una cuestión menor que una organización asociada a la unesco emita una declaración internacional de alerta sobre la situación de riesgo sobre este edificio

mal informado señor consejero el presidente en españa

para tratar sobre este edificio su presente su futuro y su protección la información con la que yo cuento que también aprovecho para preguntarle si es verdad es que

tampoco es un edificio tan importante con lo cual

del valor objetivo del edificio habida cuenta de las circunstancias por las que atraviesa de riesgo

nos gustaría saber cuáles son los planes de su departamento cuáles son en definitiva los planes de gobierno vasco en relación con este edificio su protección y garantizar
que no perdamos un bien patrimonial de estas características muchas gracias eskerrik asko

presidente andrea legebiltzarkideok gobernukideok señor sémper parlamentario del partido popular y concejal

me interpela sobre cuál es el propósito del gobierno vasco en relación a la protección del edificio bellas artes de san sebastián ante la alerta internacional emitida por icomos creo que conviene recordar nuestra relación grupo con icomos una relación que viene de antaño y que nos surge ahora al hilo del edificio bellas artes hemos trabajado con ellos y hemos pedido su opinión

o el paisaje del vino de rioja y hemos tenido también relación con ellos en diferentes momentos con respecto a este edificio de bellas artes es una relación que siempre ha sido franca e interesante para ambas partes que pensamos seguir manteniendo aunque no siempre

la última fase de nuestra relación con respecto al tema del bellas artes comenzó el pasado cuatro de septiembre cuando mediante una comunicación escrita la presidenta del comité nacional español de icomos nos hizo saber que la organización había lanzado

del patrimonio en peligro y solicitó a nuestra institución que buscara que no conlleve la destrucción del inmueble nueve días después el pasado trece de septiembre nuestro director de patrimonio cultural mantuvo un encuentro con representantes del comité español de icomos en el que les comunicó cuál era nuestra posición al respecto

yo mismo he remitido una carta a la presidenta de icomos españa

y le voy a referir las consideraciones que expongo en la carta

el departamento de cultura desde su dirección de patrimonio cultural realizó en su día una valoración positiva del valor cultural del edificio bellas artes de san sebastián razón por la que decidió dar el paso para su protección mediante la publicación de la orden de cuatro de marzo de dos mil quince por la que se resolvía inscribir

de patrimonio cultural vasco en dicha orden también se establecía el régimen de intervenciones permitidas tanto para su reforma como para su uso el informe técnico considera al bellas artes como un edificio que merece una protección de nivel medio

de un recurso judicial contra dicha calificación la propiedad había presentado previamente contra el proceso resolutivo del gobierno oponiéndose a su clasificación alegaciones que en su mayor parte no fueron aceptadas por parte del gobierno

la decisión judicial correspondiente sancionó el estado de ruina del edificio

sus decisiones al momento anterior del inicio de las actuaciones para su inscripción como bien cultural el departamento de cultura

y habida cuenta de que los informes técnicos de la dirección de patrimonio otorgaban un nivel medio de protección a dicho inmueble decidió no retomar la vía para calificar el edificio y remitir el asunto

y creo que conviene recordar en este punto que el propio ayuntamiento de san sebastián había decidido en fecha anterior concretamente en dos mil trece permítame recordar que era otra fuerza política la que gobernaba en donostia y en gipuzkoa

que el edificio tenía otorgado con el fin de abrir opciones que permitiesen nuevos usos para el mismo para terminar el repaso de estos

han dado en parte nuevamente la razón a la empresa propietaria y han provocado la situación actual como bien sabe la protección del patrimonio

interesantes y apasionados debates ahora mismo hay abiertos un par de ellos muy interesantes en diferentes ciudades del estado español en opinión de este gobierno las políticas de protección de los bienes del patrimonio inmobiliario

deben facilitar y asegurar ante todo su reutilización y su sostenibilidad en caso contrario corremos el riesgo de enfrentarnos a la pérdida completa

salvo que las administraciones públicas decidan acometer complejas y costosas operaciones de compra pública acometer obras carísimas de estricta recuperación para desembocar en uso público de dudoso interés

y tienden a dejar para el futuro situaciones de difícil gestión me temo que en euskadi ahora mismo tenemos más casos de los que podemos gestionar razonablemente

alegando que se trata de la primera edificada en los inicios del siglo veinte

pero es importante señalar que el inmueble en cuestión ha sufrido profundas transformaciones

salvo que esté equivocado su supervivencia dependerá de lo que entre todos hagamos hoy no me parece fácil que la propiedad del mismo dé continuidad a la función cultural para la que fue edificada más aún si tenemos en cuenta la evolución que el negocio de las salas del cine ha sufrido y las dificultades de supervivencia en la que dicho

como consecuencia de los nuevos usos y consumos de los ciudadanos

al ser donostia una ciudad dotada con numerosos equipamientos públicos para la cultura en cualquier caso valorar la necesidad de un nuevo

tienen representación en él por lo que respecta a la protección del edificio el departamento de cultura y políticas lingüísticas del gobierno vasco insiste en que la mejor solución

una fórmula que asegure la conservación de los elementos que sean precisos pero que a la vez permitan la protección del edificio

compaginar la protección con su adaptación a nuevos usos ya que parece inviable

habría que definir en resumen un nivel de protección permitidos que no condenan al ayuntamiento de donostia la compra pública del edificio y no impidan su reconversión para otras funciones todo ello exige

y exige también el logro de un acuerdo entre la propiedad privada y el ayuntamiento de san sebastián institución directamente implicada en esta cuestión y sin ese acuerdo no me parece fácil que encontremos una solución razonable para el bellas artes

les hemos manifestado nuestra disposición para realizar una reflexión sobre la política de conservación del patrimonio que no aboque a la parálisis de los bienes inmuebles

a sus propietarios el gobierno no puede obviar que el edificio bellas artes es un bien privado

no es de todos y creemos que el ayuntamiento de donostia es el primer interesado tanto ahora como cuando estaba gobernado por otras siglas en encontrar una salida que convine la conservación de los elementos principales del bellas artes y el inicio de nuevas actividades que permitan la supervivencia de dicho edificio por eso

es indispensable que el aayuntamiento de san sebastián y la propiedad alcancen un acuerdo que permita desbloquear esta situación eskerrik asko eskerrik asko

sí tengo cierta sensación de condena por su parte al edificio

búsqueda de elementos o de soluciones que nos permitan

dar una salida a un problema que está enquistado en la ciudad que a usted también le interpela porque como

no es algo de plato de gusto y para usted tampoco lo será ni para su director de patrimonio ni para el patrimonio vasco ni para nuestra cultura

es un además estamos hablando de un edificio y una gestión entorno a él que se viene a decir que se ve dificultado obviamente por

usted no tiene pinta de serlo yo les puedo asegurar que tampoco creemos en la propiedad privada y en la necesidad de los poderes públicos de llegar a acuerdos

por parte de los poderes público y usted decía tres frases a las que me agarro para

compartimos su supervivencia dependerá de lo que todos hagamos lo comparto y tenemos que encontrar una fórmula entonces como los que llevan intentando gestionarlos y solucionarlo

no lo han conseguido en unos cuantos años vamos a intentar aportar soluciones que no pasen por la compra no parece razonable que en este caso el ayuntamiento de san sebastián aborde

no pase tampoco por la expropiación habría que justificar además un interés público y no parece que eso sea razonable

es para que me ayude a convencer al alcalde de que hay solución de que hay salidas

a convencer al gobierno municipal actual de san sebastián de que hay una solución que pasa por una permuta

hace poco usted ha estado en el festival del cine participa el gobierno vasco en el consejo de administración

de la comunidad autónoma la diputación foral de gipuzkoa también el ministerio de cultura

de san sebastián obviamente también por qué no intentamos encontrar una fórmula

tiene un innegable interés internacional un innegable interés nacional y un innegable interés también

de proyección de películas de interés o que hayan sido premiadas en el pasado de encuentros entre cineastas de encuentros entre el cine vasco etcétera etcétera un edificio

en el centro urbano pedidas también por el propio director del festival de cine y que nos permita ser protagonistas en el mundo del cine y me atrevo a decir aunque soy de san sebastián no de bilbao pero que tenga proyección internacional a lo largo todo el año la actividad que entorno al mundo del cine se hace en donostia san sebastián y por tanto se hace en euskadi

y creo que el gobierno vasco tiene edificios en la ciudad de san sebastián infrautilizados o no utilizados los tiene el ministerio lo tiene el gobierno de españa los tiene la diputación foral de gipuzkoa

por qué no somos capaces de ponernos entre todos de acuerdo con la propiedad y a través de una permuta

dotar a la ciudad de un elemento cultural de innegable interés que además puede tener un retorno económico sustancial

desde hace muchos años yo creo que usted como es relativamente nuevo en esto del gobierno vasco puede aportar algo de frescura yo igual no tanto pero a lo mejor puedo ayudarle

al ministro de turno al diputado general y al alcalde de san sebastián resolver de una manera amigable esto con la propiedad y dotar a euskadi de una infraestructura de un innegable interés y todo el mundo contento y además con una carga patrimonial estoy convencido para el arca pública para las arcas públicas

tiene su propio consejo tiene su propia estructura no hace falta incrementarla necesitamos un edificio y su remodelación que se puede obtener con la plusvalía

del edificio fruto de la permuta y podemos resolverlo yo es que lo veo relativamente fácil ya sé que es un ya sé que es latosa la gestión que a usted le obliga a hablar con el alcalde que no quiere moverse le obliga a hablar con el ministro de turno que a lo mejor tiene otros intereses el diputado general vive muy cómodo pero bueno si superamos

presidente andrea sémper jauna yo no soy concejal en el ayuntamiento de san sebastián y usted sí

igual tiene más que decir que yo en esta cuestión a mí me parece peligroso el terreno en el que usted ha ubicado el debate

de las consecuencias de las cosas que décimos

y de su futuro va a depender de lo que muchos agentes digan y de cómo actúen muchos agentes en esta cuestión el cálculo económico más

puede estar en torno a los veinticinco millónes de euros si contemplamos solo la adquisición de una manera o de otra del edificio y su restauración

usted se da cuenta del precedente que sentaríamos estamos hablando de un edificio de primeros del siglo veinte

con una dificultad severa para que mantenga su actividad original y con un nivel de calificación medio

muchos todos somos responsables de nuestros actos podemos decidir lo que queramos pero estas decisiones tienen consecuencias y pueden funcionar como precedentes y yo tendría mucho cuidado en lo que décimos y en lo que hacemos pero bueno

su responsabilidad este edificio que tiene cien años lleva veinticinco

abandonado ahora mismo el partido nacionalista vasco gobierna en donostia y en la diputación provincial de gipuzkoa pero no siempre ha sido así hemos tenido diferentes partidos al frente de esas instituciones y ninguno

alguna dificultad entraña y luego yo le agradezco el tono propositivo e innovativo casi para hacer la propuesta que ha hecho

de donostiako zinemaldia sea hoy contar con un museo hemos ubicado las instituciones que estamos en su consejo de administración

y en tabakalera en un contexto en el que está el propio edificio cultural

está la filmoteca vasca hoy se está desarrollando la oferta cinematográfica más interesante y más rica que existe en muchos kilómetros alrededor

creo que no aportaríamos nada si hiciéramos ese intento que usted propone en el edificio de bellas artes si el ayuntamiento lo quiere hacer pues ustedes verán pero no veo yo al gobierno muy dispuesto a participar en esa duplicación de una instalación y de una actividad que está creo que perfectamente cubierta además de forma casi ejemplar por lo que dicen quienes vienen a visitarnos yo insisto

porque cualquier otra solución me parece un mal precedente

a convencer a las partes para que lleguen a un acuerdo aspiro a que el ayuntamiento y la propiedad del edificio

volvemos a tener que hablar del juego y de las apuestas deportivas una práctica que como bien sabe usted está en aumento y afecta de manera especial a la población menor de edad y a las jóvenes y los jóvenes

como así lo hemos hecho desde elkarrekin podemos en varias ocasiones que la dimensión que está tomando la proliferación de las casas de apuestas y los salones de juego es alarmante nos encontramos ante un problema de normalización en lo que respecta

cuyas consecuencias son tremendas un fenómeno social que nos concierne a todas y que preocupa y mucho no solo a asociaciones afectadas por la ludopatía

sino a la ciudadanía en general los datos existentes hablan por sí solos en los últimos años

se está extendiendo de forma exponencial por nuestras calles y barrios a día de hoy ya hay doscientos cincuenta y seis salones de juego locales de apuestas y bingos en euskadi repartidos en los tres territorios además de once mil trescientos cincuenta y uno

de las cuales algo más de la mitad están ubicadas en bares es raro encontrar hoy en día un establecimiento hostelero que no tenga un dispositivo para apostar

a este juego presencial hay que añadir el crecimiento desenfrenado de los juegos online y las apuestas deportivas sobre el que no existe una disponibilidad suficiente de datos pese a que el séptimo plan de adicciones de euskadi dos mil diecisiete dos mil veinte reconoce sus riesgos para la población joven pero sigamos con los datos que sí tenemos el veintiséis por ciento de la población vasca ya es jugadora activa al haber gastado dinero al menos una vez a la semana

en algún tipo de juego de azar los ciudadanos y ciudadanas más jóvenes de euskadi se están convirtiendo en el blanco más fácil para las empresas de juego y en las más perjudicadas por el serio problema de salud pública que supone la propagación de la ludopatía la oferta del juego se presenta cada vez

con la consiguiente exposición de las alumnas y alumnos al juego y a la normalización de una actividad que puede desembocar

de euskadi han reconocido haber hecho apuestas deportivas y un cinco por ciento podría tener un problema grave con esta práctica y estar en riesgo de desarrollar una adicción al juego y las asociaciones que combaten la ludopatía y que llevan trabajando desde hace décadas

en un contexto de invasión de la publicidad que incita a jugar y hacer apuestas usando como reclamo

desde las instituciones para poder abordar y regular el problema del juego

en las plataformas digitales y en los medios de comunicación sin ningún tipo de limitación

es imposible encontrar un evento deportivo que no se encuentre saturado antes durante y después por anuncios de apuestas deportivas en la actualidad diecinueve de los veinte clubs

lucen en sus camisetas una publicidad de este tipo sus anuncios son continuos en la publicidad estática de la mayoría de los estadios o pabellones deportivos con la intervención de conocidos presentadores periodistas y deportistas que le dan

consiguiendo hacer un todo donde es muy difícil distinguir las críticas y debates deportivos de la promoción de las apuestas

se hinchan de beneficios provenientes de apostantes muchas de cuyas familias terminan unidas en la miseria con la trillada frasecita

pretenden cínicamente salvar la propia trasladando el problema al eslabón más débil que es la persona que juega la cara más amarga de esta realidad

las que presentan un trastorno de juego patológico según el departamento de salud del gobierno vasco y cada vez

actualmente el perfil de personas que acuden a las asociaciones a solicitar ayuda por problemas con el juego tiene entre veintiséis y treinta y cinco años en el caso de los hombres y entre treinta y seis y cuarenta y cinco en el caso de las mujeres

solo consiste en pasar dinero de unas manos a otras está organizado garantizando el máximo beneficio para el que lo explota y la pérdida para el que lo juega

a las tres empresas que se dedican a las apuestas deportivas en euskadi y

unas cifras que no dejan de crecer como décimos las dos variantes de apuestas deportivas que han experimentado mayor crecimiento estos últimos años el juego online

son donde estas empresas y plataformas digitales obtienen grandes beneficios ya que en su mayoría están radicadas

sin olvidar también que los pocos puestos de trabajo que generan son de baja cualificación y desde elkarrekin podemos estamos convencidas de que la proximidad de las casas de apuestas

son elementos determinantes que facilitan la consolidación de la conducta adictiva además la inmediatez en conocer el resultado y en disponer del premio aún más se ceba en particular con los estratos sociales de menos recursos que se agarran al juego como la única salida para huir de la cruda e injusta realidad que le rodea

en los barrios obreros periféricos asociados por tasas de paro muy elevadas ubicándolas cerca de centros educativos y del ocio buscan atraer a una juventud

y carente de alternativas con las que desarrollase seducida por el supuesto dinero fácil como los controles de acceso en muchos casos son laxos

no es inhabitual en algunos barrios por las mañanas en los recreos los adolescentes

que albergan dispositivos para apostar incluso se constata que adolescentes se citan

y en este tipo de espacios para ver juntos partidos de fútbol y partidos deportivos y disfrutar de los precios populares y las ofertas engañosas en lo que respecta a las consumiciones quieren que pasen allí el mayor tiempo posible comiendo y bebiendo aún a pérdidas porque el negocio

el fin último pasa por convertir las apuestas en algo social y normalizado si consigues integrar las apuestas en la vida social

estamos ante el granero del juego patológico la ludopatía se instala como un impuesto a la pobreza o como algunos ya califican

y claro ante esta situación las movilizaciones y protestas generadas desde diversas asociaciones juveniles colectivos sociales

ante este panorama desolador se multiplican

la ludopatía que es un trastorno reconocido por la organización mundial de la salud sus consecuencias son alarmantes no solo para la persona que las padece sino para el entorno familiar

puesto que la encuesta periódica euskadi y drogas que lleva a cabo el gobierno vasco

y expertos en adicciones y las asociaciones de ayuda a la ludopatía de euskadi esta situación como ya hemos venido denunciando

que las instituciones públicas tomen cartas en el asunto con medidas eficaces y a la altura del problema medidas concretas que respondan a las necesidades de un fenómeno como el del juego

asuma un papel protagonista en la materia y eso es lo que venimos hoy a reclamarle señora beltrán de heredia ante la falta de estudios concretos y datos

y del número de personas afectadas por las consecuencias negativas que derivan de su práctica en euskadi los partidos de la oposición entre ellos elkarrekin podemos solicitamos la creación de un observatorio del juego como uno de los primeros pasos a dar para realizar de forma periódica encuestas y estudios

sobre el que trabajar para abordar esta problemática hace un año

de los grupos de la oposición aprobó un decreto para la creación del observatorio vasco del juego un órgano cuyo objetivo principal es

se elaboraría un plan de acción con propuestas y medidas concretas estamos viendo cómo desde entonces sigue aumentando notablemente el número de salones de apuestas y con ello el número de personas

y durante este año qué medidas concretas se han puesto en marcha desde su departamento qué informes y estudios se han realizado desde el observatorio del juego

qué se ha hecho para poner en marcha medidas que protejan a las personas más jóvenes de las consecuencias negativas del juego y las apuestas deportivas tanto desde el observatorio del juego

que hay que abordar con medidas concretas eskerrik asko

de entrada el número máximo de licencias que se pueden conceder en cada modalidad de juego como usted bien sabe los datos que le voy a citar ahora es la radiografía que tenemos hoy de la actividad el juego en euskadi

de las tres licencias posibles de casinos hay dos que están en funcionamiento de momento no hay más demanda del aforo total de juegos de bingo no están autorizadas ni la mitad de las plazas también con una clara tendencia a la baja para salones de juego el reglamento de dos mil dieciséis estableció un máximo de doscientos diez licencias hasta entonces hasta que se aprobó el reglamento sabe usted que no había ningún límite máximo

faltan seis de apertura y queda claro porque así lo recoge el reglamento que no se puede conceder ni una licencia más en tanto en cuanto no se cierre

hay tres licencias de casas de apuesta le recuerdo además en este sentido que somos la única comunidad del estado que concede estas licencias por concurso

en total se han habilitado treinta y cuatro locales específicos de apuestas

desde la puesta en marcha de las medidas reguladoras se está produciendo una reducción del número de máquinas de juego las denominadas comúnmente como tragaperras esas que están en los bares y establecimientos hosteleros en la actualidad siete mil cuatrocientos setenta máquinas en un total de aproximadamente catorce mil bares o locales hosteleros la tendencia

en los tres últimos años un trece por ciento menos menos del diez por ciento del número de bares y establecimientos hosteleros

con una ligera tendencia a la baja también en este caso con estos datos

el juego presencial en euskadi está regulado bien regulado y controlado pero evidentemente más allá del juego presencial

el que se practica sobre todo desde ámbitos particulares y privados las tres licencias de casas de apuestas de euskadi tienen su dimensión online porque aquí se exige que pare disponer de una licencia

pero más allá de lo que nos corresponde regular y que podemos controlar evidentemente hay una realidad más generalizada universal por el propio carácter de internet al igual que la publicidad sobre el juego el juego online

sino solamente de canales de difusión incitación directa al juego generando también mayores problemas en el ámbito privado y en el ámbito familiar como usted ha comentado

muy visibles y registrables en la red pero que al menos inicialmente son poco visibles y detectables en el entorno más cercano es una de las

al juego de muchas familias y también de la administración pero por eso hay que hablar en este caso también de una preocupación compartida preocupación social familiar educativa institucional y en este sentido el reglamento que se aprobó en dos mil dieciséis ya en ese reglamento establecimos todo un capítulo dedicado a la publicidad al patrocinio a la actividad promocional a todo lo que tiene que ver con la difusión y promoción del juego todo el capítulo

evidentemente también los propios medios de comunicación pueden regular

lo ha hecho recientemente eitb desde su responsabilidad social corporativa ha tomado la decisión de suprimir la publicidad del juego de su programación como bien saben

de la real sociedad votando a favor de que el equipo renunciara a patrocinios de empresas de juego pero también es verdad que no nos tenemos que engañar estamos en unas fechas en las que la publicidad de determinados juego de azar florece especialmente con intensidad

la aceptación social son un hecho el estado no tiene ninguna regulación que limite la promoción del juego en internet o la promoción en medios

está aconsejando una autorregulación ante esto el departamento de seguridad qué hemos hecho hemos abogado siempre por intensificar otra línea fundamental de trabajo una labor continuada orientada a la prevención desde la comunicación desde las campañas de sensibilización y desde acciones formativas

divulgativas jornadas de formación tanto dirigida a policías locales desde el punto de vista

locales de juego también en cuanto cumplimiento de horarios pero también dirigidos a personal

hay situaciones en las que se observa a personas con prácticas de riesgo y en este sentido también estamos colaborando con asajer la asociación alavesa de

desarrollen iniciativas de concienciación y prevención en el ámbito escolar recordar que este programa en el último curso llegó a más de cuarenta mil escolares el próximo martes se celebra el día sin juegos de

incidiendo en la necesidad de la prevención y la concienciación social la sensibilización personal y la necesidad de insistir en actitudes de responsabilidad ante el juego estos días estamos emitiendo desde el departamento también mensajes por radio diciendo con el mensaje si juegas con responsabilidad

que menores jueguen y también quiero destacar la labor de control la labor sancionadora ante el incumplimiento de la normativa que

en colaboración con las patrullas de protección ciudadana de las comisarias también con las policías locales y la propia dirección de juego y espectáculos

más de mil doscientos inspecciones específicas para detectar infracciones

de menores en salones de juego el resultado han sido doce expedientes sancionadores por la identificación de dieciséis menores esto acarrea una multa a las operadoras entre cuatro mil y seis mil euros por cada

en cualquier caso coincido con usted en que todas las medidas que se puedan adaptar tanto desde la regulación como desde el control sancionador o incluso

cuando el impacto del juego afecta negativamente a las relaciones sociales y familiares de las personas lo que

actuar y para adoptar medidas correctoras pero al mismo tiempo también sin caer en actitudes demagógicas que pretendan simplificar

absolutas de persecución o de prohibición por eso ha sido importante la creación del observatorio de juego de euskadi un observatorio que se constituyó el catorce de febrero

que ya está ejerciendo su labor de vigilancia de prospección y estudio de las tendencias del sector y de sus repercusiones económicas y sociales un observatorio

de trabajo para codificar clasificar y categorizar los datos en esto también somos pioneros en la creación de este observatorio y en la composición multidisciplinar del observatorio datos que después deberá analizar y tomar en consideración la comisión técnica asesora de juego para que finalmente y como consecuencia el consejo de juego y la autoridad reguladora adopte las medidas más adecuadas para la gestión pública de

eskerrik asko señora beltrán de heredia por las explicaciones

es evidente porque ya habíamos tenido la oportunidad de debatirlo en otras ocasiones

que hay decretos pero también es verdad que el problema del juego sigue creciendo y ustedes por ejemplo han constituido el observatorio del juego que

y sigue sin ofrecer un estudio de la situación

que ustedes crean porque es la oposición

por lo tanto me alegro de que se esté trabajando pero lo que le estamos diciendo es que se apremie porque la situación es complicada y la situación ahí fuera evidentemente es grave para muchas familias

por el problema que es la ludopatía si no asociaciones de vecinos asociaciones de jóvenes que entienden

son competencia del estado central algunas porque

algunas cuestiones publicitarias desde el gobierno vasco no puede ser que la respuesta sea siempre que no es competencia nuestra sí

y con el juego presencial de competencia autonómica

es de sobra conocida la vinculación de algunos partidos y de algunas organizaciones políticas con los principales operadores del juego

o en los lobbies del propio sector además la atención al tratamiento de la adicción se deja casi exclusivamente

que perciben escasas subvenciones y que también están reclamando ayudas un aumento de las personas que acuden a ellas se hace imprescindible de manera urgente bajo nuestro punto de vista ordenar el sector regulando la publicidad de forma similar

como el tabaco o el alcohol prohibiendo la participación en sus anuncios de personas relevantes separando el contenido de los programas de la publicidad estableciendo un control efectivo de acceso a los salones y a los propios

y mediante diferentes medidas

que protejan a las jóvenes y a los adolescentes y a las personas que tienen prohibidas además una serie de distancias mínimas entre un centro educativo y el salón de juego y el propio espacio entre los salones de juego

de revisar y de actualizar ese reglamento del que usted me habla además es de vital importancia ofrecer los jóvenes alternativas deportivas sociales culturales y de ocio con las que desarrollarse equiparando

trasladando un porcentaje a su tratamiento y prevención mejorando los servicios evidentemente de inspección y usted citaba las intervenciones de la ertzaintza con los mil setenta y tres controles y los doce expedientes sancionadores

uno cuando pasa o sale a cualquier centro o salón de juego hay muchísimos menores en ellos los hay

y paralelamente a eso también hay que desarrollar campañas que vayan más allá de cuatro frases apelando la responsabilidad individual es evidente que hay campañas que hay medidas lo que le estamos pidiendo es medidas más concretas que estén basadas en los datos actualizados que entendíamos que desde hace un año había habido tiempo

empiezan a verse esporádicos episodios de organización y de resistencia

ante esta nueva droga que son los salones de juego y fíjese quién se beneficia con el juego media docena de empresas que ni crean empleo ni sus beneficios revierten en la nuestra sociedad

y que poco después perderán de una forma u otra y de eso se trata de ganar al principio para perder casi siempre el juego se ideó precisamente así

en las instituciones para paliar los efectos de este fenómeno y hemos presentado diferentes iniciativas en los ayuntamientos por ejemplo y en otras

adoptar medidas concretas más medidas eso es lo que estamos interpelando agradecemos su buena intención pero creemos que los órganos como el observatorio del juego tiene que empezar a funcionar

presidente andrea volvemos otra vez al debate de quien fue primero

francamente me da igual quien se ponga la medalla pero está claro que el observatorio se creó el decreto se aprobó en el mes de noviembre y un decreto lleva muchos meses de elaboración por tanto quiero decirle con esto que el departamento había empezado a trabajar ya con antemano aunque ustedes

constitución de este observatorio del juego un observatorio que tiene carácter transversal e interdisciplinar formado por distintas representantes de distintos departamentos del gobierno que en estos momentos como le he dicho está inmerso en la elaboración de trabajos de estudio de análisis de impacto económico de impacto fiscal del sector

el nivel de implantación de políticas de igualdad en las empresas del sector y muy especialmente el impacto social del juego el impacto en los colectivos más vulnerables en los menores de edad en personas en riesgo de juego

y lo está haciendo en colaboración con una asesoría especializada en investigación social en definitiva lo que queremos y este es el objetivo es conocer mejor la realidad de los juegos de azar

venimos aplicando o en otras que convenga activar el departamento tiene el compromiso de elaborar para dos mil veinte una nueva planificación del juego como así lo establece

que está abordando en los que está trabajando este observatorio precisamente que darán

de esa planificación es en tanto

acciones de formación que se deben llevar a cabo acciones de sensibilización prevención

precoz en el ámbito escolar la responsabilidad social corporativa exigible a las empresas del sector en el sentido de ir mucho más allá del mero cumplimiento normativo

compromiso ético políticas de igualdad por parte de los agentes implicados en el sector aspectos de mejora en la gestión de los datos estadísticos que venimos manejando exploración también de

incrementar la seguridad y la trazabilidad de los y las usuarias y un mayor conocimiento de las actividades complementarias que rodean el mundo del juego pero el observatorio se constituyó el catorce febrero a usted le puede parecer que es tiempo suficiente para haber hecho todo este trabajo pero le insisto y le pido paciencia dejemos que el observatorio

observatorio nos traslade en sus conclusiones ya por adelantado nos han comentado

página web que ya está en construcción y que va a servir para dar visibilidad a los estudios y a las encuestas que se realicen sobre aquellos datos que son más relevantes en el sector y que más preocupación social por tanto no estamos partiendo de cero el observatorio no es un punto de arranque desde la nada el departamento de seguridad con la dirección de juego y espectáculos y la propia estamos en observación y vigilancia permanente en estrecha y continua colaboración con otros departamentos con otras instituciones colaborando con entidades locales con policías locales con asociaciones y personas afectadas

al juego pero sobre todo y vuelvo a insistir en el estado somos una de las comunidades que más exhaustivamente ha regulado

observación análisis vigilancia preocupación sí insisto todo eso sí

realidad y de la capacidad práctica de articular políticas eficientes

con una preocupación compartida y con un trabajo

día a día y con un compromiso de ofrecer también respuesta a esta preocupación eskerrik asko eskerrik asko beltrán de heredia